muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari la ley de iniciativa

regula la forma de participación legislativa de los ciudadanos de euskadi ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se aprobó una ley que en nuestra opinión se ha demostrado durante todo este tiempo excesivamente restrictiva para la participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria y que en todo caso se quedó vieja

actualizada es una ley claramente insuficiente y obstaculizadora para atender y facilitar el deseo actual de participación política de los ciudadanos es decir que teníamos una ley vieja que

a los nuevos tiempos durante los últimos tiempos la ciudadanía ha demostrado modo u otro su descontento con las imperfecciones y las estrecheces del sistema democrático y ha mostrado su deseo de participar directamente en los asuntos públicos a partir de estas reflexiones upyd registra una proposición de ley para actualizar esta ley el objetivo es facilitar la participación de los ciudadanos

mejorar los instrumentos ya existentes para acercar las instituciones a los ciudadanos y propiciar o facilitar su participación en los asuntos públicos

que los ciudadanos y los grupos sociales tomen parte en la función legislativa haciendo más sencillo que puedan proponer y defender

por el parlamento vasco representante último de los ciudadanos legezko proposamen honen helburuak

se trataba por lo tanto de acercar la política a los ciudadanos de regenerar y ensanchar la democracia de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida

puedan participar en la vida parlamentaria que los ciudadanos entiendan que el parlamento es suyo no un lugar extraño o lejano a sus intereses y propuestas obviamente para lograr estos objetivos

suficiente habrá que proponer otras reformas y otras medidas esto es lo fundamental que he aprendido durante estos años de trabajo parlamentario los partidos políticos son indispensables pero el cambio de verdad que necesita la política es que de verdad los partidos políticos antepongan los intereses de los ciudadanos a los suyos propios y que piensen siempre

del país habitualmente la verdad es que esto no ocurre cuáles eran las propuestas iniciales de esta proposición de ley presentada en su momento por upyd la reducción de treinta mil a seis mil firmas

del número de firmas necesarias para firmar presentar una iniciativa legislativa popular ampliación de los temas sobre los que pueda versar una ilp por ejemplo que pudiera presentarse una ilp que tuviera como objetivo la modificación del régimen electoral vasco entre otras temáticas

explicar y defender su propuesta en pleno ponencia y comisión la reducción de los obstáculos para que una ilp pueda ser tramitada es decir que una

impidiera la presentación de una ilp que pudiera versar sobre el mismo tema

que puedan firmar una iniciativa legislativa popular y la utilización de la firma electrónica en la suscripción de apoyos a la ilp entre otras eran las medidas que nosotros pretendíamos incluir en esta reforma legal casi todos los objetivos los hemos alcanzado las firmas necesarias para presentar una ilp serán finalmente diez mil

en el pleno comparecer en la ponencia si lo pide una mayoría de grupos volver a defender la propuesta en la comisión parlamentaria

en el que se apruebe la modificación legal definitiva pudiendo dar su opinión sobre los cambios finalmente alcanzados además se han reducido en parte

pueda ser tramitada y los extranjeros podrán firmar una iniciativa legislativa popular estos son los objetivos que hemos alcanzado por lo demás

realizado en la ponencia y los acuerdos alcanzados que permiten que finalmente vayamos a tener una nueva ley de iniciativa legislativa popular

y facilitadora de la indispensable participación de la ciudadanía en la vida política y parlamentaria

y muchas gracias a todos los grupos por su participación en este muy interesante debate y en los logros alcanzados gracias eskerrik asko maneiro jauna

señorías buenos días a todos y efectivamente la proposición no de ley instalada en la cámara desde el comienzo de la legislatura con una

hoy ve la luz digo

va a ser dos veces o ha sido dos veces dictaminada en comisión

llama la atención pero bueno el asunto es que por fin verá la luz distintas reuniones de ponencia y un trabajo realizado por todos para mejorar la iniciativa legislativa popular y sobre todo con ese

utilización y de acceso de los ciudadanos a este tipo de iniciativa política que desde luego que necesitaba una reforma está claro que lo importante debe de ser la actuación parlamentaria pero esa capacidad ciudadana va avanzando en todo tipo de instituciones

es decir un instrumento la iniciativa legislativa popular que completa la acción parlamentaria y tenemos que decir que la enriquece nosotros

de ley presentamos en su día a los artículos no era una ley

materia que tenía que regular suficiente presentamos once enmiendas las enmiendas con las del resto de grupos han tenido

transadas aceptadas otras retiradas en función de la normal negociación legislativa y de los acuerdos alcanzados entre unos grupos y otros

pensamos que lo hacemos por seguridad jurídica y en ese sentido mantenemos esa enmienda

dice que en relación con la legitimación que están legitimados para ejercer la iniciativa legislativa popular

y estén inscritos en el censo electoral y punto el artículo uno de la ley va un poco más allá a parte de esta consideración

asimismo estarán legitimados para ejercer dicha iniciativa legislativa popular las personas que no estando privadas de sus derechos políticos y contando con la edad mínima establecida en la legislación electoral para ejercer el derecho al sufragio estén debidamente inscritos como domiciliados en el padrón de algún

comunidad autónoma del país vasco y tenga la condición de ciudadanos de un estado miembro de la unión europea residan legalmente de acuerdo con la normativa de la materia de extranjería pensamos que no hay seguridad jurídica en esta segunda parte del artículo uno nosotros hubiesemos concretado la legitimación en relación con la condición política de vascos

las elecciones a esta cámara y en ese sentido pues es la discrepancia una discrepancia jurídica en cualquier caso y que

votar a favor de lo que sea el conjunto de la ley también efectivamente se ha regulado pensamos pero bueno hemos asumido y lo hemos aceptado que hay una hiper representación de la comisión promotora que

en relación con ese trabajo con el trabajo a partir de la iniciativa legislativa popular una especie de hiper representación en todo el iter del trabajo legislativo en relación con la iniciativa pero bueno la mayoría de los grupos lo han

lo aceptemos pensamos que poco aporta tanta presencia de un colectivo que ya tiene efectivamente

ahí está el acuerdo y nosotros lo asumimos y votaremos a favor en definitiva una proposición de ley el señor maneiro en su día y que le pisó la iniciativa al gobierno como recordábamos en la toma en consideración de la lectura del criterio

y que hemos trabajado en ponencia y en comisión en comisión por dos veces también desde el diecisiete de octubre del dos mil trece casi tres años tomada en consideración ya ven ustedes una ley importante y también compleja jurídicamente que ha tenido casi tres años de tramitación paradójicamente otros proyectos de ley

y complejos jurídicamente no corren esa misma suerte de poder tener un debate sosegado sostenido y sin prisas que amarre el acuerdo parlamentario cuatro

enmiendas se concedieron a esta proposición es decir catorce artículos y con normalidad condujeron

a que el acuerdo haya presidido este momento de su tramitación da que pensar esta cuestión no es cierto señorías pues bien con la salvedad del artículo

votaremos a favor del texto dictaminado en comisión y presentado en su día
por el grupo upyd muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

egokian kokatzea eta horretarako sarrera txiki benetan txiki bat egiten dut como ustedes ya me conocen sabrán que me gusta plantear en los debates

y como esta podría ser mi última intervención en pleno no quisiera perder la oportunidad de hacerlo con algo tan importante como es la participación del pueblo en la política y en las instituciones aunque les prometo que seré breve y espero que en la legislatura siguiente se dé pie a nuevos debates tan interesantes como el que se abrió con esta iniciativa de modificación de ley

bere definizio klasikoa hartzen badugu oinarri ya que no se plantea en ningún momento crear espacios de información debate y decisión ni tan siquiera de codecisión ciudadana esto es otra cosa en última instancia son los grupos políticos aquí representados

de que lo que se propone sea respetado incluso mejorado por los grupos o por el contrario el derecho al enfado con los grupos políticos que utilizan las iniciativas legislativas populares para llevar el ascua a su sardina y no respeten el espíritu inicial

eso como siempre entra dentro de la responsabilidad de los diferentes grupos políticos la democracia participativa es un medio

a recoger las iniciativas de la ciudadanía sino que la democracia participativa asume un compromiso extra de empoderar y respetar las decisiones ciudadanas sobre diferentes asuntos

dadin venimos a mejorar sustancialmente una de las poquísimas rendijas que permite este modelo de democracia delegada para que la ciudadanía tome parte en los procesos legislativos nada más pero nada menos también como dije en la comisión espero que nadie de los aquí presentes entienda que con este amplio avance vamos a solucionar la crisis del sistema en el que estamos imbuidos ni vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas aunque tal y como dije en aquella comisión

que hoy abrimos una de las puertas del parlamento a toda la ciudadanía en relación a la ley diré que la lectura que realizamos desde euskal herria bildu en relación a los puntos que proponíamos nosotras y nosotros como enmiendas al texto original con intención no solo de mejorarlo sino de favorecer puntos de encuentro entre los grupos que aspirábamos a transformar la anterior ley y que tal y como se puede ver en el texto final han sido incorporados es la siguiente y queríamos que así constase hemos conseguido junto con otros grupos traer la rebaja de los límites de la recogida de firmas han pasado de treinta mil

no era lo que proponíamos en un principio desde euskal herria bildu ya que proponíamos una bajada todavía más considerable

en dos tercios la exigencia inicial y que hoy la ciudadanía tenga más facilidades para poder presentar iniciativas legislativas populares que las que tenía anteriormente y sobre todo que los límites que se puedan poner en este caso a nivel de números dejen de serlo o por lo menos sean menores

de los que hemos podido disfrutar en esta otro de los avances es que antes dichas iniciativas solo podían firmarlas las personas inscritas en el censo y hoy ya son las personas inscritas en el padrón municipal las que pueden participar dentro de todo este proceso

sino que también abre un debate muy interesante de cuál debe ser el papel político y los derechos políticos activos

que deben tener estas personas no solo en relación a la ilp sino en todo el devenir político y en las decisiones que toman las instituciones del lugar en el que viven

noticia que también espero que venga acompañada de muchas más en este sentido y avancemos en el reconocimiento total de todos los derechos políticos para todas las personas independientemente

se ayuda con medios físicos no únicamente económicos a que las personas o al comité promotor de la iniciativa legislativa popular puedan utilizar espacios públicos municipales

llámense ayuntamientos o llámense otras instituciones públicas empezando por este mismo parlamento para poder recoger

y acabando con las trabas puramente burocráticas lo que ayudará a tomar una conciencia y opinión sobre lo que se propone desde la iniciativa que se pretenda traer a este parlamento otro de los puntos que nos parece muy importante y así ha quedado reflejado en el artículo dos

no todos los temas pueden ser recogidos o se pueden tratar a través de las iniciativas legislativas populares en política se puede y se debe hablar de todo sí pero todo aquello que pretenda limitar los derechos económicos sociales o políticos de la ciudadanía vasca tiene un límite aquí y ese límite lo ha puesto euskal herria bildu

por pretender violar los derechos de nuestros y nuestras vecinas de gasteiz

el mayor logro a mi entender y también como enmienda de euskal herria bildu es el que el comité promotor no solamente pueda recoger firmas traerlas al parlamento

con voz y dándonos su opinión en cada uno de los procesos de tramitación de la futura ley lo cual como he dicho antes nos parece que hoy abre una puerta más para la participación

debates en base a iniciativas legislativas populares para hablar de pensiones dignas de sueldos mínimos dignos de derecho al trabajo a una vivienda digna una propuesta de ley que avance en los derechos de conciliación familiar una propuesta de ley que sirva

a mí se me ponen los pelos como escarpias de imaginarme a las personas

que vengan aquí defiendan en esta cámara la razón de su petición participen en el trabajo de la ley y posteriormente puedan cantar las cuarenta o cantarnos las cuarenta si ustedes y nosotros no cumplimos con las exigencias que esas personas traigan a esta cámara y lo mejor esas personas

tendrán el derecho de hablarles desde el mismo sitio que lo hago yo ahora la verdad es que solo por eso creo que ha merecido la pena esta ley bukatzeko

prozesua errazteko y para concluir agradecer a los grupos la disposición de llegar a acuerdos creo sinceramente que este es un buen acuerdo y que abre la puerta a otros nosotras y nosotros votaremos evidentemente a favor de esta ley y tal y como hicimos en la comisión anterior mantenemos nuestra enmienda

con lo cual nos abstendremos tanto en el artículo uno dos cuatro y cinco que era donde manteníamos enmiendas propias que fueron retiradas para favorecer el acuerdo

sí gracias presidenta brevemente para volver a repetir que la aprobación de esta iniciativa es un éxito político innegable

que va a permitir una mejor y mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos creo por lo tanto que podemos

registrado esta iniciativa hace ya algunos años en concreto hace casi tres años la pregunta es qué es lo que ha podido ocurrir para que la aprobación de esta iniciativa

lenta en el tiempo en comparación con otras leyes que se aprueban en semanas pero en todo caso creo que podemos sentirnos satisfechos el señor barrio hablaba de hiperrepresentación de la comisión parlamentaria de la comisión promotora

que tiene que ver con el parlamento vasco tanto en la comisión como en la ponencia yo creo que es un éxito creo que está muy bien es decir cuando

una iniciativa legislativa popular se registra lo lógico y normal es permitir

presentar su propia iniciativa en el pleno explicar qué es exactamente lo que se pretende para que de primera mano los grupos podamos escuchar cuáles son sus reivindicaciones

muy positivo lo extraño es que esto no se haya hecho antes teniendo en cuenta que estamos ya en el año dos mil dieciséis no veo ningún problema sino todo lo contrario en que esta comisión promotora además pueda participar en los trabajos de la ponencia cuando hay una mayoría

solicitan para que esta comisión promotora pueda participar ahí y explicar también a los grupos cuáles son sus planteamientos y tampoco hay ningún problema sino todo lo contrario para que esa comisión promotora pueda explicar también sus posiciones en la comisión parlamentaria correspondiente e incluso posicionarse en relación

o en relación a los argumentos de los demás grupos es algo bueno para todos es enriquecedor es bueno escuchar a la comisión promotora

o críticas al no haber aceptado quizás en algún caso

y que cierre el debate también los miembros de la comisión promotora en el pleno nos parece también que es un gran avance es decir no hay que tener miedo a escuchar a la ciudadanía de primera mano no solamente lo que

en el parlamento ya sea en la comisión en el pleno o en la ponencia esto es algo muy positivo hay que quitarse por lo tanto el miedo no hay que tener miedo a que nos lleven la contraria no hay que tener miedo a escuchar por parte de la comisión promotora que no

de la misma forma que nosotros representantes políticos tampoco debemos tener miedo en poder posicionarnos en algún caso en contra

que pudiera llegar a presentarse el propio señor lópez de munain por una parte decía que la iniciativa digamos es insuficiente y que en última instancia serán los grupos políticos los que decidan las leyes que se aprueban pero por otro lado hablaba de un límite establecido por los propios grupos en relación a determinadas iniciativas legislativas populares efectivamente eso es la democracia representativa

nosotros escuchamos y en base a eso planteamos nuestros argumentos evidentemente esta medida este cambio legal

otro tipo de reformas esto no va a salvar la democracia ni en euskadi ni en españa pero creo que es una ley muy importante que

de todos los grupos incluso con la aprobación de esos grupos que inicialmente se mostraron claramente en contra de algunos de los postulados que incluía esta iniciativa y que finalmente van a ser aceptados en eso consiste también la política intentar convencer al resto de grupos y dejarnos también convencer cuando sus argumentos pues podamos ver que puedan ser interesantes hace algunos días y hablando de temas pendientes de reformas pendientes de cambios pendientes en la política

un amigo después de las elecciones del domingo reflexionando sobre los resultados de estas elecciones me decía

me roban a que me desgobiernen yo creo que el cambio político esencial

como en españa es que efectivamente los ciudadanos voten libremente a todos esos representantes políticos que tienen como objetivo mejorar la democracia

a alguien decir prefiero votar a quienes me roban a que me desgobiernen creo que habremos avanzado mucho ese sí que sería un cambio sustancial

en todo caso y al margen de reflexiones filosóficas gracias a todos los grupos por su trabajo durante todos estos meses y gracias por su apoyo

argumentos planteados en la ponencia y en la comisión gracias eskerrik asko maneiro jauna barrio jauna euskal talde popularraren ordezkaria zurea da hitza
sí gracias señora presidente y desde el escaño porque voy a ser muy breve

esta última reflexión del señor maneiro interesante y decirle y contestarle en relación con lo que yo calificaba de hiper representación de la comisión promotora yo creo que sí hay una hiper representación se traslada y proyecta

lo que va a ser el trabajo parlamentario desde el inicio pero a lo largo de todo el trabajo parlamentario y pensamos

minimiza un tanto el trabajo de quienes hemos sido elegidos para hacer esa función legislativa en relación con esa cuestión efectivamente el impulso de ese tipo de iniciativas pero yo pienso que ese camino

la ponencia o la comisión parlamentaria pienso que está hiper dimensionado sobre dimensionado en cualquier caso nosotros lo vamos a apoyar es decir nosotros vamos a apoyar ese protagonismo pero entendemos que

las firmas para esa iniciativa legislativa popular va a ser mucho más flexible va a ser mucho más fácil mucho más dinámico ya
la cuestión la iniciativa de por sí isiltasuna mesedez y en ese sentido pues era

que se ha tenido que hacer en función del acuerdo del avance de este tipo de iniciativas parlamentarias pero pensamos que

un poco en esa cuestión muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

hemos aprobado con un gran consenso la proposición de ley de modificación de la ley de iniciativa legislativa popular ocho barra mil novecientos ochenta y seis es una proposición de ley cuya toma en consideración se aprobó en octubre del dos mil trece

que en realidad han contribuido a mejorar el contenido desde el punto de vista técnico y del consenso político como ha podido verse en la votación en los treinta años transcurridos desde que se aprobó la ley

aparte de los avances tecnológicos uno de los aspectos en los que más ha progresado nuestra ciudadanía es en su formación lo que sin duda acrecienta carácter crítico y exigente con la administración

entre la administración y la ciudadanía elevar en realidad la calidad de nuestra democracia los socialistas nos hemos comprometido con ello cuando estuvimos en el gobierno

que fue pionero en fomentar la transparencia en la administración en estimular la participación de la ciudadanía

en línea con estas acciones afrontamos el desafío de actualizar mejorar

y con espíritu de colaboración y consenso hemos trabajado la proposición de ley hoy aprobada

no debe estar reñida con la participación ciudadana en los asuntos públicos creo sinceramente que el objetivo se ha cumplido en líneas generales posiblemente unos hubiéramos querido ir más allí y otros se hubieran quedado más atrás

pienso que es un valor en sí mismo los socialistas hemos visto reflejadas las diez enmiendas que hicimos al texto

y se han reflejado nuestras iniciativas fundamentalmente en tres aspectos en el texto aprobado

que en la iniciativa legislativa popular participen no solo la personas con derecho a voto en nuestra comunidad

los requisitos de ser miembros de países de la unión europea o residan legalmente en la comunidad autónoma vasca de acuerdo con la normativa en materia de extranjería y esto pensamos porque insisto era una de nuestras enmiendas

participen de las iniciativas que puedan considerar interesantes para facilitar estas iniciativas populares se ha rebajado la exigencia de firmas a diez mil desde las treinta mil vigentes también nosotros proponíamos

perfectamente reflejados en el texto final también se ha querido impulsar la participación y la defensa de las iniciativas

otro objetivo que también se había marcado el partido socialista por eso se ha regulado su presencia tanto en pleno como en comisión y ponencia habilitar cauces para que en este mismo parlamento puedan expresarse las opiniones y valoraciones de los promotores nos parece también un avance importante en conclusión

en la mejora de la calidad de nuestra democracia quiero resaltar la disposición al diálogo de todos los portavoces en la ponencia lo cual ha merecido como resultado que en esta legislatura hayamos concretado este avance para posibilitar la participación ciudadana

en las primeras intervenciones se ha referido a la demora que ha sufrido esta ley y que es cierto porque como también se ha dicho esta ley fue

un primer dictamen fue aprobado el cinco de junio del dos mil quince durante un tiempo durmió en el limbo de los justos

que gracias al impulso del portavoz del grupo nacionalista señor zorrilla y de mí mismo impulsamos el punto final

de esta ley ampliando el consenso que se había conseguido en junio de dos mil quince y también como digo posibilitando la aprobación final que hemos hecho hoy muchas gracias

y sí que es bueno reflexionar a veces nos atacamos con que la tramitación parlamentaria

catorce artículos que ha estado tres años durante tramitación y a pesar de los avatares aunque no está el señor maneiro

y algunos periodos de hasta seis meses pues cada uno que reflexione de quién es responsabilidad este retraso finalmente como decía el señor unzalu esta

y con un amplio consenso como decía se inició esta proposición como una modificación de la ley de iniciativa legislativa popular la ley ocho barra mil novecientos ochenta y seis de veintiséis de junio es decir que este pasado domingo cumplió treinta años

se ha convertido en una nueva ley de iniciativa legislativa popular vasca

en esta materia y cuyo objetivo creo que compartido por todos los grupos parlamentarios es atender a una demanda social

en este aspecto en la labor de iniciativa legislativa dice mucho que de las cuarenta y cuatro enmiendas inicialmente presentadas únicamente dos se han mantenido para este pleno una del grupo popular y otra de eh bildu con lo cual creo que es evidente el importante grado de consenso alcanzado en esta materia brevemente respecto a la enmienda del grupo popular al artículo uno hemos votado en contra porque

no solo a los inscritos en el censo electoral y respecto a la enmienda de bildu al artículo dos también hemos votado en contra

y también hay normativa estatal y europea que establecen unos límites generales que hay que respetar no obstante parte de su enmienda como bien sabe se ha dado cabida en el artículo dos lo relativo

lo referente a la apelación genérica que hacían a los derechos subjetivos que creo que no han calibrado bien los posibles efectos que ello pudiera tener nuestro grupo

llegamos a un acuerdo que ha hecho que retirásemos las dos enmiendas que inicialmente habíamos reservado relativas a la composición

y a la participación de la misma en la tramitación parlamentaria creo que aportando en este aspecto

eta hainbat aspekturen arteko oreka garrantzitsua lortu dugu brevemente porque se ha repetido aquí resumiríamos las novedades más importantes que introduce esta nueva ley en cuatro aspectos se rebaja el número de firmas o apoyos necesarios de treinta mil a diez mil

los diez mil que planteaba inicialmente este grupo con unos factores correctores territoriales para que no fueran cuestiones puramente locales al estilo de lo que hace el reglamento europeo en esta materia

pues al final creo que hemos llegado a una cifra diez mil que comparado

con otras comunidades con otros estados creo que es razonable y racional lege honen berritasun nabarmenetako bat da

en segundo lugar se abre el abanico a otras personas para que puedan firmar las iniciativas cualquier ciudadano o ciudadana

siempre que pertenezca a algún estado miembro de la unión europea o resida legalmente en euskadi es decir no solo las personas inscritas en el censo electoral vasco sino todas las personas que viven y trabajan en euskadi

en la participación de los promotores durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa

racionalidad a la hiperrepresentación de la que hablaba el señor barrio un equilibrio que por cierto necesitará de su correspondiente adaptación

y finalmente se recoge la aplicación de las nuevas tecnologías con la posibilidad de la firma electrónica y la protección de datos personales así como la actualización de las cuantías de las subvenciones bukatzeko

bermatzeko legea hoy volvemos a debatir en este parlamento la toma en consideración de una iniciativa para modificar la ley dos mil ocho de veintitrés de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social la

prácticamente un año casi un año fue rechazada en este parlamento pero hay que recordar que era una iniciativa que tenía el respaldo

orain dela ia urtebete pero muchos ciudadanos siguen queriendo que se refuerce y mejore

en euskadi herritar askok euskadin babes sistema hobetu eta indartzea nahi du por eso el grupo popular hoy vuelve a traer

esa voz que fue silenciada en su momento como decía hace apenas un año

ciudadanos porque creemos que es en esta cámara donde estamos representados los ciudadanos

hacerse eco de las preocupaciones reales de los ciudadanos jarraitzen dugu sinesten komenigarria dela herritarrak kezkatzen

sobre una cuestión que inquieta preocupa a ciudadanos a ciudadanos a secas sin etiquetas ya se les ignoró una vez y pedimos hoy que en este parlamento no les ignore por segunda vez komenigarria eta

abrir un debate sereno allá donde el propio gobierno ha reconocido que existen deficiencias señorías porque es este gobierno el que ha reconocido

de las ayudas sociales le ha costado pero finalmente

de los datos este gobierno empezó rechazando cambiar el sistema

de sus propios datos de los datos oficiales que iba remitiendo a preguntas fundamentalmente del grupo popular en este parlamento

de prestaciones sociales mostrando incluso su disposición a reflexionar sobre la rgi para mejorar el sistema

el señor toña que recogió el relevo al señor aburto también comenzó diciendo que la rgi debía ser actualizada para luego ya

y finalmente el propio viceconsejero de empleo cuestionó la ineficacia de lanbide al asegurar que sus hijos

en lanbide para buscar empleo entre otras cosas porque poco se encontraba

en un arrebato de pragmatismo que se le debió de pasar pronto

porque más control en las ayudas sociales era más justicia social estas son las cosas que nos han ido diciendo el gobierno y los miembros del gobierno hasta el propio lehendakari los

de inicialmente rechazar cualquier modificación y cualquier reflexión en el sistema vasco de protección con el objeto de mejorarle con estos precedentes desde luego no entendemos el criterio desfavorable de un gobierno que ha admitido que las cosas no funcionan no compartimos los escasos argumentos de este gobierno a la hora de posicionarse en contra de esta iniciativa

porque no se trata de poner en cuestión el sistema sino todo lo contrario se trata de mejorarlo y reforzarlo

de garantizar que nuestro sistema de protección pueda corregir sus ineficiencias y que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan

ahora la excusa que se nos pone de manifiesto en

que el gobierno lleva un tiempo trabajando en una comisión técnica que está identificando aspectos a mejorar y que realizará un informe de recomendaciones en breve

que ustedes ya reconocieron no al principio de la legislatura que rechazaban hacer cualquier modificación pero ya ante la evidencia de los datos cuando se rindieron ante la evidencia de los datos

que estos deberes ustedes los hubieran hecho antes lo que sí es cierto es que la verdad tampoco tenemos muchas esperanzas en un gobierno que prácticamente ha llegado tarde y mal

que se va a aprobar en esta legislatura a pesar de retorcer incluso

de esta cámara por otra parte por eso décimos que a buenas horas a buenas horas ustedes constituyen esa comisión técnica

que traemos que se puede abrir con la aprobación de esta iniciativa

para el debate de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular el propio gobierno en sus argumentos de criterio desfavorable también a esa ilp decía que se pretende modificar lo que se aprobó por el parlamento vasco hace poco menos de siete años

en el tiempo como para permitir una evaluación de las medidas adoptadas o sea parece ser que ustedes han cambiado de criterio porque hace un año no podía revisarse

como digo constituir esa comisión técnica que vayamos a saber cuándo conocemos sus conclusiones y esas recomendaciones y por dónde van esas recomendaciones

contradictoria con el criterio manifestado los argumentos esgrimidos por este gobierno para no dar curso a la iniciativa legislativa popular pero nuevamente excusas señorías

propios datos por eso hacemos hoy un nuevo llamamiento a la reflexión y a la responsabilidad de todos los grupos con representación en esta cámara y que dejen de dar de una vez por todas la espalda a la realidad de los hechos esa realidad que como decía nos han ido describiendo los datos

puede obviar con un sistema que alcanza la cantidad de ciento treinta y tres millónes de euros de cobros indebidos de los que apenas se ha recuperado el trece por ciento con un sistema que se producen situaciones abusivas que están ahí y tampoco se pueden ignorar y por lo tanto hay que atajar

en lanbide que apenas llega al tres coma dos por ciento muy lejos de ese cinco por ciento que era el objetivo

y con un sistema que ya ni el propio gobierno ni nadie reconoce como válido para la búsqueda de un empleo tal y como reconoció el propio viceconsejero de empleo miembro de este gobierno volvemos a recordar porque creemos

que este sistema es uno de los más avanzados no solo de españa sino del resto de europa el gasto en euskadi representa el cuarenta por ciento del total

y la mitad del presupuesto del departamento de empleo y políticas sociales va destinado a sufragar estas prestaciones

cuatrocientos sesenta y uno millónes presupuestados en el año dos mil dieciséis los mismos que en el año dos mil quince eso sí hay que recordar que en el año dos mil quince

que habilitar treinta millónes de euros más para satisfacer las necesidades y para satisfacer como digo las obligaciones al configurarse la renta de garantía de ingresos como un derecho subjetivo la rgi atiende a ciento treinta y seis mil personas

para nosotros para el grupo popular el sistema de protección es imprescindible desde luego es indispensable como herramienta de cohesión social y de lucha contra la pobreza pero en es en los momentos de crisis económica

hay que garantizar más la sostenibilidad del estado de bienestar para atender precisamente esas situaciones de necesidad que se puedan ir produciendo y es ahí

correcta y lleguen a las personas que realmente lo necesitan compartimos como no podía ser de otra forma con miles de ciudadanos la preocupación por salvaguardar los derechos de los más débiles porque se corrijan las deficiencias detectadas y se eviten situaciones abusivas esa es la razón

la presentación de la presente iniciativa porque la solidaridad y la justicia social son principios que constituye la seña de identidad de nuestra sociedad y reforzar los mecanismos de solidaridad pasa por corregir esas injusticias las injusticias de aquellas personas que actualmente se quedan fuera del sistema

aparte de la vivienda habitual una sociedad desde luego con verdadera vocación solidaria debe extender la protección a las personas más vulnerables como es el caso de las personas mayores con dificultades y sobre las que además ha caído el peso de la crisis económica haciendo de sostén

la existencia de fraude de abusos es la mayor muestra de insolidaridad por ello es responsabilidad de los poderes públicos arbitrar

para atajarlo y la verdadera solidaridad también consiste en dar una oportunidad a las personas que cobran ayudas sociales

y no se cronifiquen y se les ofrezca la posibilidad de tener un trabajo ustedes señorías mucho me temo que hoy van a hacer oídos sordos otra vez a miles de ciudadanos que quieren un sistema más justo

y corrija las injusticias que permita reforzar

en momentos de especial dificultad no se trata de endurecer los requisitos de acceso al sistema dejando fuera los derechos de los más débiles es justo lo contrario se trata de garantizar

y más solidario hoy señorías tenemos la oportunidad de abrir un camino para la reforma del sistema de protección en euskadi corregir esas disfunciones

y ponerlo definitivamente al servicio de la empleabilidad e impulsar la cohesión social y señorías es una mera cuestión de voluntad política

incluso a retorcer el reglamento de esta cámara e ir en contra de los usos de esta cámara para hacer posible que dos proyectos de ley

en el mes de julio creo que no valen más excusas en demorar

y que todos ustedes además en múltiples declaraciones

de esta legislatura que hoy acaba han reconocido que iniciar incluso el propio gobierno por lo tanto no entendemos por qué a la hora de la verdad ustedes van a volver a dar

señorías ustedes hoy tienen la oportunidad de hacerlo pero no se crean que esto es para contentar al pp que nos dirán que llevamos con el raca raca insistentemente esta legislatura y habría que recordarles que bastantes legislaturas en más no en vano además llegamos a un pacto con el partido socialista cuando era lehendakari patxi lópez la señora

para tratar de mejorar el sistema eso es lo que pedimos nuevamente mejorar el sistema cuando están detectados los déficits vemos claramente que el sistema no sirve a los objetivos que tiene encomendados en la propia ley que es dar oportunidades a las personas y darles un empleo por lo tanto con la negativa esto no es para contentar al partido popular

si ustedes reflexionaran darían paso a la tramitación de esta iniciativa me imagino que muchos

satisfechos estarían satisfechos de su clase política que esperan desde luego de nosotros más

político por eso señorías aunque creo que no va a ser así apelo nuevamente a la reflexión a la responsabilidad

y que todos ustedes de alguna forma han reconocido unos más y otros menos y hasta el propio gobierno en múltiples declaraciones y declaraciones muy taxativas y contundentes ha señalado que las empresas pasan de lanbide o que lanbide es absolutamente ineficaz para encontrar un empleo

sí muchas gracias presidenta son varias las razones por las cuales vamos a votar en contra de la iniciativa planteada por el grupo popular por un lado

material para que pueda ser debatida y acordada por lo que

también por otro lado demostrado que el partido popular no tiene intención de debatir y acordar nada en relación a esta cuestión sino que lo único que pretende es hacer

populismo se llama por lo tanto esta sería la segunda razón para votar en contra de esta iniciativa que la presentación de esta iniciativa tiene un solo objetivo un objetivo electoral tratar de conseguir votos ahora que se acercan las elecciones autonómicas

recientemente es reproducción casi exacta de la ilp

ya fue rechazada por este parlamento una iniciativa que no fue silenciada sino que fue rechazada

de grupos no fue silenciada sino que fue debatida y el resto de grupos incluido un servidor planteamos una serie de argumentos para votar en contra de aquella iniciativa por lo tanto no fue silenciada sino que fue rechazada

ya se ha puesto en marcha una comisión técnica en el seno del departamento de empleo y políticas sociales que está identificando los aspectos a mejorar

un informe de recomendaciones en breve por otro lado la única pretensión de esta iniciativa más allá de los argumentos expuestos por la señora garrido

podamos compartir o incluso que algunas de las mejoras que dice defender nosotros podamos compartirlas lo cierto es que la pretensión que observamos en esta iniciativa que está redactada es endurecer los requisitos para acceder

a la llamada pobreza energética lo que por cierto podría solucionarse

de las pensiones y en concreto de las pensiones más bajas competencia estatal que el gobierno del partido popular se ha negado a impulsar durante los últimos años

su inserción social la señora garrido denuncia que efectivamente falla en eso pero luego cuando vemos las propuestas que se plantean en esta iniciativa no hay ninguna propuesta concreta para mejorar la empleabilidad

al propósito de garantizar la sostenibilidad del individuo

donde principalmente falla el sistema tampoco se propone ninguna medida concreta por lo tanto en general rechazamos todas las modificaciones que plantea el partido popular

y otras digamos que no vemos que tengan

necesario sino más bien todo lo contrario pero ya digo que en general son medidas que pretenden endurecer el acceso e incrementar las obligaciones por lo tanto nosotros no podemos votar a favor iniciativa en la exposición de motivos el grupo popular dice algunas cosas interesantes que todos los grupos podemos compartir sin ningún tipo de dudas el asunto es que luego ya digo al presentar las modificaciones concretas pues va hacia el endurecimiento de los requisitos y hacia el endurecimiento del propio sistema en lugar de tratar de ampliar

exposición de motivos como por ejemplo que el fraude y los abusos

e injusto que puede existir dentro de las políticas sociales y deben ser erradicados

el fraude y los abusos deben ser erradicados de la vida política y también el fraude fiscal y la corrupción generalizada o institucionalizada que padecemos en el conjunto de españa entonces yo aquí a los miembros del partido popular les debía recordar

el caso pokémon la gürtel bárcenas bankia

la caja b o la amnistía fiscal eso sí que es un auténtico fraude

millónes de euros de dinero público durante los últimos años de hecho hay un estudio reciente elaborado por la universidad de las palmas que cifra

euros el gasto que nos ha supuesto al conjunto de los españoles tanto la mala gestión

anuales consecuencia principalmente de la corrupción es ahí donde sí que habría que incidir si atajáramos no solamente el fraude fiscal que supone aproximadamente sesenta mil millónes de euros anuales en el conjunto de españa sino que atajáramos de verdad

institucionalizada ahí sí que tendríamos mucho más dinero público señora garrido para destinarlo a la educación a la sanidad

ha planteado una lucha contundente contra la corrupción política sino que durante los últimos años la ha protagonizado y esto evidentemente también debe recordarse

un mayor fraude que los recortes sociales que ustedes han aplicado contra la sociedad durante los últimos años señora garrido porque usted repite permanentemente

que ustedes han aplicado y es la corrupción que ustedes aunque no solo ustedes han protagonizado durante los últimos años y yo creo que en ello debería centrarse el grupo popular por otro lado señala en la exposición de motivos el grupo popular que se debe defender aún con más la existencia de una norma que garantice los derechos a las personas que más lo necesitan y garantizar una mayor y mejor cobertura

económicas nosotros también en este punto estamos de acuerdo puesto que ustedes gobiernan en muchísimas comunidades autónomas españolas yo les animo humildemente a implantar un sistema semejante al de la rgi en esas otras comunidades autónomas puesto que aquí

si lo defienden hagan todo lo posible para implantar sistemas semejantes en el resto de comunidades autónomas en lugar de venir aquí a plantear el endurecimiento de determinados requisitos en fin señora garrido mejorar el sistema que sí con la participación de todos los grupos con el mayor consenso y con la mejor de las voluntades políticas el sistema tiene errores que pueden ser perfectamente modificados y desde luego lanbide tiene mucho por hacer en relación a todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo para esas personas que están cobrando la rgi y sin embargo

de ese círculo hay muchas cosas que mejorar pero ustedes no proponen nada relevante para mejorar sino todo lo contrario estas son las razones que nosotros planteamos estas todas estas que son cerca de diez todas estas son las razones que nosotros

votamos en contra de la toma en consideración de su iniciativa nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz

gracias señora presidenta por una parte señor maneiro agradecerle el tono porque desde luego no ha surtido el tono incendiario y a la vez

anterior se conoce que usted en un año ha tenido tiempo para madurar ciertas cuestiones tanto las que competen

seguramente otras cuestiones y algunas se han reposado y por lo tanto han hecho que usted haya salido a este debate en un tono más tranquilo lo cual sinceramente yo creo que no se lo agradezco solo yo sino también el resto de la cámara

excusa muy excusilla diría yo porque la otra vez había tiempo suficiente señor maneiro y usted votó en contra por lo tanto no me venga ahora con la excusa del plazo

legislativa popular por cierto luego a usted se le llena la boca de participación ciudadana que le lleva ese argumento incluso a reducir

y resulta que luego aquí a la hora de la verdad silencia o da un portazo

que querían simplemente mejorar y reforzar el sistema de protección en euskadi por lo tanto creo que

o en demasiadas ocasiones iniciativas que parece que quedan muy bien iniciativas de escaparate

rebajar el requisito

y que luego silenciara la voz de esos ciudadanos con su voto en contra a dar trámite a iniciar simplemente el debate

tiempo habría usted sabe tan bien como yo que usted ha tenido que ayer presentar enmiendas a dos proyectos de ley

que ha incumplido sus propios compromisos del calendario legislativo que de veintinueve luego fueron treinta y uno proyectos de ley comprometidos a día de hoy solo se han aprobado once

que este gobierno ha tenido que retirar cinco proyectos de ley el último ayer mismo ante el fracaso que iba a tener hoy en esta cámara por lo tanto señor maneiro tiempo podría haber

para tramitar dos proyectos de ley porque han querido varios grupos con representación en esta cámara concretamente el partido nacionalista y bildu si

si nos creemos realmente lo que hemos dicho o nos hemos creído por una parte los datos y lo que hemos sostenido los distintos portavoces

usted ha sido crítico con el servicio vasco de empleo y con los resultados del servicio vasco de empleo por lo tanto creo que en consecuencia hubiera sido o sería lo oportuno dejar que se abriera el debate luego ya veremos por dónde transcurre el debate pero es que ustedes hoy votando en contra de la toma de consideración de esta iniciativa lo que hacen es hurtar el debate

la voz de miles de ciudadanos que quieren que las cosas cambien

ni somos populistas y además ni lo necesitamos yo creo que eso ha quedado meridianamente claro además a raíz de los resultados del pasado domingo y cuando usted me dice es que lo que hay que hacer es que el sistema cumpla con el objetivo de la empleabilidad pues claro que sí eso es algo que hemos nosotros sostenido

por eso hicimos modificaciones concretas con el partido socialista y lo hemos mantenido a lo largo de estos tres años pero para que el sistema

funcione la premisa inicial es que en el sistema estén las personas que realmente tienen que estar

están en el sistema y deberían de salir porque no cumplen los requisitos o están cometiendo abusos que las hay o aquellas personas que se quedan fuera

un trastero aparte de la vivienda habitual y actualmente con la regulación existente se queda fuera por lo tanto nosotros lo de endurecer los requisitos no buscamos que el sistema obedezca a lo que tiene que obedecer que es a un criterio de justicia

lo repite hombre podría enumerar también los que tenemos cerca que a veces ya

cerca digo por una cuestión de proximidad y mire precisamente porque esta ha sido una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos ha sido el partido popular el que ha tenido la valentía de aprobar un paquete de medidas a lo largo de esta legislatura para precisamente combatir

esté donde esté esté en el partido que esté y venga de donde venga esperemos que

por lo menos en sus discursos políticos apruebe esa

el partido popular en los próximos años yo finalmente termino diciendo

una oportunidad pero la vuelven a perder los ciudadanos aquí no pierde el partido popular nosotros

proponiendo este tipo de iniciativas porque creemos que son las iniciativas que necesitamos creemos

en un momento en el que claramente el funcionamiento de lanbide está cuestionado que el propio gobierno lo ha cuestionado que lo hemos criticado que no da resultados que estamos viendo

la diligencia de las distintas administraciones para que ese dinero llegue realmente a las personas que lo necesitan yo por eso lamento que hoy una vez más no se oiga la voz de esos ciudadanos

es oír la voz de tantos ciudadanos que simplemente plantean que se abra un debate para mejorar y reforzar un sistema sin duda un sistema en el que creemos

sí muchas gracias presidenta señora garrido usted y ustedes pueden presentar esta misma iniciativa o cualquier otra tantas veces como

ningún problema en que cada vez que haya elecciones locales o autonómicas ustedes presenten una iniciativa parecida

siempre lo hago yo en solitario en el turno en contra porque me gusta

las cosas cara a cara en lugar de dejar mis explicaciones para después y tal y disimular

de esta iniciativa usted ha estado hablando durante tres o cuatro minutos en relación al plazo esta es una

para votar en contra de esta iniciativa porque la presentación de esta iniciativa tal día

no tanto que no hubiera tiempo para aprobar las modificaciones que fueran necesarias sino que sobre todo lo que evidencia es que ustedes no tenían intención de que esta iniciativa saliera adelante es decir que era una iniciativa claramente

no sé si mi discurso o mi tono suele ser incendiario yo creo que más bien no pero en todo caso las argumentaciones que he planteado yo son las razones que explican por qué votamos en contra de esta iniciativa

no necesitamos plantear ninguna excusa para votar a favor o en contra de ninguna iniciativa si una iniciativa nos gusta votamos a favor si vemos que no nos gusta votamos en contra no no son excusas igual las excusas las pueden poner otros que tienen pues responsabilidades en el gobierno o que les afectan otro tipo de

y ya digo he explicado las razones por las cuales votamos en contra de esta iniciativa esta iniciativa si la compara con lo que hemos debatido anteriormente justo plantea lo contrario nosotros planteamos una iniciativa para facilitar la participación ciudadana lo que plantean es una iniciativa para endurecer determinados requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos nosotros lo que queremos con la iniciativa anterior de reducción de firmas

cuantas más iniciativas legislativas populares mejor lo cual no quiere decir que nosotros vayamos a aceptar todas que vayamos a dar el nihil obstat a todas ellas no sino que los ciudadanos puedan tener la posibilidad de defender sus iniciativas en este parlamento y luego ya

los que decidamos por lo tanto estas son las razones fundamentales algunas de las cosas que usted plantea en relación a lo que hay que corregir de la ley las compartimos

de lanbide hay otras modificaciones que usted ha planteado en otras ocasiones que podrían ser razonables y que otros grupos las plantean pero en general lo que vemos es que ustedes plantean

en el acceso a las ayudas incrementan los años de empadronamiento incrementan las obligaciones plantean los trabajos a la comunidad

las plantean para este tipo de ayudas pero no para otras en fin

en fin plantea al menos dudas muy serias constitucionales y hablan también de lo que tiene que ver con la pobreza energética

es modificar y mejorar el sistema de pensiones incrementar las pensiones incrementar las pensiones mínimas esa es la forma más directa más razonable de que nuestros pensionistas puedan vivir por otro lado plantean retirar la ayuda a quienes manden

al extranjero es decir si lo uno se lo gasta en alcohol no pasa absolutamente nada pero si se lo manda al extranjero cosa que además es difícil de controlar

las medidas propuestas es electoralista y usted decía que hemos perdido una nueva oportunidad yo creo señora garrido que usted

electoralista y en ese sentido ya ha aprovechado su oportunidad

en relación a los casos de corrupción señora garrido me pedía que numerase los más cercanos a la comunidad autónoma vasca o los casos de corrupción que siguen vivos o que se han producido en euskadi y yo he querido enumerar los que afectan

es tan larga que posiblemente harían falta incluso horas para citarlos todos he citado los casos de corrupción política que afectan al partido popular porque es el partido popular

en conclusión señora garrido usted tiene todo el derecho a presentar esta iniciativa nosotros

pero nosotros tenemos muchas razones de peso para votar en contra de esta iniciativa gracias eskerrik asko maneiro jauna

los socialistas vascos nos hemos opuesto a la reforma que plantea el pp precisamente porque consideramos que hay que mejorar nuestro sistema de protección social y lo que propone el pp señora garrido no es mejorarlo es seguir poniendo el dedo en muchas cosas que el propio partido ha podido solucionar y no ha querido

creemos que hay que fortalecer el sistema vasco de garantía de ingresos frente a quienes pretendan recortarlo

nos ratificamos en que se están poniendo de manifiesto nuevas situaciones de dificultad no previstas antes de la crisis

cuantos mecanismos sean necesarios para que no haya ni un solo euro público que lo reciba quien no debe recibirlo eso por cierto es lo que viene a decir la proposición de ley

en el articulado no hay ni una sola medida ni una sola

el fraude que denuncian porque poner coto al fraude que haya aunque sea reducido ni siquiera requiere cambiar la ley

por otras vías como la colaboración entre lanbide y la ertzaintza puesta ya en marcha o por un mejor control de la documentación

que ha regentado el pp para evitar falsificaciones de las que se valen las mafias o que todas las administraciones se dejen de pruritos en la gestión de datos y se interconecten que lanbide sepa al instante si una persona demandante de ayudas

si percibe otros ingresos eso significa que el gobierno central el gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos faciliten esa conexión automática

con otro fraude el fiscal pero lo que trae el pp es otra cosa pretende seguir engañando al presentarse como los defensores de los débiles y hace algo más

a personas que hayan sido condenadas por determinados delitos supliendo la pena que los jueces

por cierto algo ha dicho hoy el tribunal constitucional en relación con un caso parecido diciendo que es

agravar una pena ya impuesta curiosamente sin embargo no excluye a quienes han sido condenados por cometer fraudes u otros delitos extraordinariamente graves corrupción evasión fraude fiscal es decir excluye a quienes han cometido un delito

quienes hayan sido condenados por corrupción y mantengan a buen recaudo fortunas en suiza o panamá nosotros estamos a favor de luchar contra el fraude el social que representa un porcentaje ínfimo por cierto y el fiscal y el de la economía sumergida sumidero por el que se nos van

también estamos a favor de luchar contra quienes utilizan herramientas que pudieran llegar a ser legales pero que son en realidad un fraude como hemos visto con los papeles de panamá

también estamos a favor de reforzar los derechos sociales y que lleguen a quien ahora

hay una razón de peso añadido a nuestro rechazo y es

porque cada movimiento que han hecho ustedes en esta materia ha seguido puntualmente el calendario electoral en vísperas de las elecciones municipales iniciaron el proceso de la ilp

trajeron esta que debatimos cuando va a comenzar la campaña de las autonómicas curiosamente desde octubre del dos mil quince hasta mayo del dos mil dieciséis han pasado siete meses en los que el pp no ha considerado oportuno plantear este debate

y termino dando la razón al pp tiene razón debiéramos de tener un debate sereno sobre nuestro modelo de protección social pero es el pp

y análisis sobre lo que debatir y sí es verdad el gobierno una vez más lo ha dejado para cuando cierra el parlamento sin tiempo

tanto a la hora de concederlas y retirarlas como en su función de inserción y lanbide es el instrumento para hacerlo pero el gobierno sostenido por el mismo partido que la pasada legislatura que decía que esto se arreglaba en cuatro meses

hasta dos años después de llegar al gobierno y el resultado un fracaso de gestión como reconoció por cierto el responsable de lanbide el viceconsejero de turno cualquier crítica a la gestión no justifica señora garrido plantear un debate falso que parte del supuesto

que se atribuye falsamente a colectivos inmigrantes y que da como resultado una propuesta que de forma falsa dice plantearse para acabar con el fraude

por eso nosotros defendemos un sistema de protección social sin fraudes y por eso nos oponemos a este fraude de propuesta eskerrik asko pastor jauna

errenta podríamos hablar largo y tendido sobre el fraude fraude político

podríamos hablar de escuchas telefónicas a adversarios políticos utilizando su poder institucional podríamos hablar de ladrones de ladronas de todo eso podríamos hablar

a favor de acabar con ciertos fraudes no están dispuestos o dispuestas a terminar con otros eh bildu siempre se ha posicionado en contra de todos los casos de fraude

en la pasada legislatura recortes que dejaron fuera a miles de perceptores y perceptoras

unos recortes instaurados para asegurar la buena vida de algunos y algunas mientras miles de personas se quedaban y se quedan fuera de la cobertura social todo ello en un país donde supuestamente lo primero son las personas por lo tanto

al menos cambios que sirvan para ampliar derechos lo que sí hemos visto sin embargo es que mientras aquí parece que estamos pensando cómo modificar el sistema

una herramienta que servía para garantizar la cohesión social y evitar desigualdades según caritas por lo tanto eh bildu tiene la certeza de que si todos y todas estuviéramos a favor

para no dejar a gente en la miseria y para lograr una sociedad más justa

malintencionadas excluyentes y absolutamente interesadas que solo buscan rédito político amaitzeko lege proposamen honen alde

hartzen dugu txostena nuestro grupo está dispuesto a examinar de forma sosegada todos aquellos aspectos que puedan ser mejorados y que no supongan recortes porque a pesar de que usted en su discurso ha dicho que no

lo que hacen es endurecer los requisitos de acceso a la misma por lo tanto este grupo está dispuesto a examinar

todos aquellos aspectos que puedan ser mejorados en la tramitación y gestión de la rgi

de la ley dieciocho barra dos mil ocho pero tenemos igualmente claro que dicho análisis hay que hacerlo fuera de periodos electorales de los focos mediáticos

protagonismos partidistas fuera de demagogias dejando a un lado toda la demagogia y el populismo hemos de trabajar todos los grupos juntos

hemos de sentarnos e intentar el mayor consenso posible porque una modificación de esta importante ley bien merece el esfuerzo para ser aprobada con amplia mayoría

por unanimidad por lo tanto una vez finalizado el estudio del equipo técnico creado a instancia del departamento de empleo y políticas sociales

nuestro grupo se compromete de cara a la siguiente legislatura a abordar los aspectos a mejorar de la ley dieciocho barra dos mil ocho reiterando

han de hacerse de forma sosegada fuera de los focos mediáticos con voluntad de conseguir los consensos más amplios posibles por parte de todos y de todas

malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos

malditos quienes dicen estar contra el impuesto al sol como dice el partido nacionalista vasco pero que luego hacen informes y votan leyes que establecen un impuesto al sol que establecen un impuesto al autoconsumo eléctrico

por lo tanto es razonable que pague por ese respaldo sin embargo se pueden considerar que estos peajes

quienes hacen autoconsumo se benefician del respaldo que les da el sistema por lo tanto tienen que pagar un peaje por ello hori da gure galdera

gracias presidenta y buenos días a todos pues en lo que tiene que ver con la energía acabamos esta legislatura casi como la empezamos reconociendo la necesidad de un debate y compromiso en todas las políticas energética y de hechos por parte del gobierno vasco bastantes pocos

unos meses en octubre de dos mil quince este también es uno de los temas que aúnan voluntades en el momento de las votaciones pero cuya ejecución

a cabo partimos de dos debates como digo uno en el año dos mil trece y el último en octubre de dos mil quince los compromisos que se exigían eran tanto al gobierno de españa

el partido popular en madrid hizo realidad un real decreto que solo ellos defendían y aquí en euskadi el compromiso contra ese real decreto murió con la votación vota pero no cumple el punto cuatro de aquella transacción decía

en el caso de que entré en vigor el real decreto mencionado el gobierno vasco analizará propuestas concretas para favorecer el autoconsumo de energía eléctrica se supone que quien lo vota se lo cree porque obviamente de quien no está de acuerdo no esperábamos ni esperamos nada y en esta ocasión

los socialistas vascos defendemos alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en dos mil cincuenta

más adelante como digo en ese octubre de dos mil quince en ese último debate decidimos aumentar los niveles de exigencia además de mostrar nuestro rechazo al real decreto

el grupo parlamentario socialista mantiene su posición de reforma de dicho decreto y defiende la necesidad de un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala

porque el real decreto implica que además de pagar los peajes como decía el señor maeztu al sistema como cualquier otro consumidor

paguen además un impuesto al sol extra por el mismo derecho a utilizar la red que el resto de consumidores

todo esto el día que conocemos a través de los medios de comunicación que ya de forma definitiva y una vez pasadas las elecciones generales volverá a subir la factura

y ganaran los de siempre por otra parte exigíamos la presentación de un informe de situación al menos un informe

probablemente el portavoz nacionalista en su intervención nos explicará la razón del no informe

al eve una modificación de ayudas que tampoco ha tenido el recorrido esperado pero conociendo la política energética dirigida por la señora tapia tampoco esperábamos el cumplimiento aunque entenderíamos entonces que se votará en contra pero el pnv en lo que tiene que ver con la energía siempre nos habla del compromiso

del debate de la política energética del futuro y por eso se creó en esta cámara una ponencia creo que es el foro donde el pnv pudiera haber demostrado efectivamente que van

es decir que no mueren el día que pulsan el botón de a favor y qué decir de la ponencia un foro presidido por el partido nacionalista vasco

colectivos que trabajan en el sector para a partir de ahí poder pactar entre todos las futuras políticas energéticas para euskadi esa ponencia como digo presidida por el pnv pero no solo presidida

se ha bloqueado y se ha paralizado la ponencia por parte del partido nacionalista vasco nunca le interesó a este gobierno ni al partido que le sustenta este debate en términos serios para el grupo socialista es otra oportunidad perdida para poder pactar el futuro de la política energética de esa que llena programas electorales pero que a la hora de la verdad no hay nada sigue habiendo un bloqueo por parte de este grupo nacionalistas vascos

mientras el resto de las comunidades autónomas aumentan en normativas en la concienciación de un cambio de políticas y en los compromisos concretos euskadi mira para otro lado nos da grandes titulares en foros donde se presentan de forma propagandística

pero a la hora de la verdad nada hemos perdido una oportunidad

por parte de todas las fuerzas políticas para entre todos convenir qué era lo mejor para este país y ustedes lo han bloqueado

es que una vez más votaron a favor de la creación de esa ponencia para evitar las presiones externas las presiones políticas por parte de los grupos parlamentarios que entendíamos que era un tema que debíamos

en este tema y que cada vez tienen más protagonismo en la calle esto también sucedió con el tema de la pobreza energética o con la ilp del fracking votos en torno a una cosa y ejecuciones cero el debate de la política energética como digo debiera ser un pilar fundamental para cualquier gobierno una política en la que existiera una coherencia entre lo que se defiende en la tribuna se escribe en los programas electorales

un compromiso obligado a la hora de ejecutarlo y no es porque lo diga esta cámara es una cuestión de respeto a la cámara y yo creo que el partido nacionalista vasco debiera hacer

todos los grupos de esta cámara a excepción del pnv traen incumplimientos por parte de este gobierno a la hora de llevar a cabo mandatos parlamentarios

es una demanda que va más allá de los discursos que todo lo aguantan hacen falta compromisos y políticas concretas que digo ha sido referido al último acuerdo parlamentario al que podemos añadir también el anterior el del año dos mil trece hoy añadimos además un punto más porque nosotros no cesamos en nuestro empeño de que efectivamente esto sea tomado en consideración por parte del pnv y además hoy pedimos que se elabore una ley

es algo que siempre es ese mantra que utilizan para posicionarse en contra de algo

para decir nosotros aquí no podemos hacer nada porque esto es competencia de madrid ustedes conocen que la comunidad autónoma de murcia ya ha hecho algo con este tema nada más y nada menos que murcia que está gobernada por el partido popular

y ustedes seguramente la causa para decir que no votan la ley

y estamos ante la misma situación que hace cuatro años muchos debates

por parte de quienes nos hemos empeñado en que esa ponencia funcionara hemos escuchado a colectivos y personas implicadas en el tema de la energía que han sido traídas a esta cámara por parte de todos los grupos parlamentarios

de llegar a un dictamen consensuado al menos en los mínimos y al final esta legislatura acaba tirando todas esas actas a la basura porque esta ponencia no va a ir a ningún sitio y hago mucha incidencia en la ponencia

para luego no hacer nada y entonces esta parlamentaria y mi grupo parlamentario estarán dispuestos a escuchar las explicaciones que ustedes nos van a dar el por qué no hay un informe

de decir continuaremos con las políticas esas que nunca se hacen y esperaremos también a ver si usted nos da luz a todo esto que no han hecho y no tengamos que esperar a que

y mientras el parlamento europeo saca los colores a españa por entorpecer el autoconsumo

el solar impulse dos el avión propulsado exclusivamente por energía solar cruzó la semana pasada el océano atlántico desde nueva york y aterrizó en sevilla

mientras las sociedades avanzadas caminan en una electrificación mayor de nuestra sociedad y su gran reto es el transporte como el ejemplo de suecia con una experiencia piloto creando una autopista eléctrica

en españa por el contrario se camina en sentido contrario castigando a nuestras industrias con unas tarifas eléctricas abusivas

deteriorando aún más el clima de inversión en renovables en españa nuestra apuesta como partido nacionalista vasco

donde las instalaciones estén dentro del sistema eléctrico y no fuera donde podamos aportar y recibir energía y ser retribuidos por ello actualmente incluso al margen del gobierno

y el sector eléctrico están participando en un grupo de trabajo y análisis en el que por primera vez están presentes todo el sector energético eléctricas tradicionales renovables cogeneración

para analizar la situación actual del sistema eléctrico y poder ofrecer unas bases comunes para una nueva regulación eléctrica

este es el objetivo a corto y medio plazo conseguir entre todos los actores grupos políticos incluidos cambiar la regulación eléctrica a nivel estatal que es donde reside la competencia como una operación a corazón abierto y no pretender colocar una tirita y perder el tiempo pidiendo al gobierno vasco que legisle donde no es competente

a mediados de julio del dos mil quince plataforma por un nuevo modelo energético ya nos propuso un texto para proceder a realizar esta declaración aprobación del real decreto fieles a este compromiso con esta plataforma por un nuevo modelo energético nuestra enmienda transaccional fue la misma que nos trasladó la misma plataforma yo creo que eh bildu y el grupo socialista deberían de tomar ejemplo de esta plataforma

qué dicen los legisladores murcianos y ahora recientemente el tribunal constitucional les ha dado la razón ese artículo veinte bis

aíslan físicamente y dejan exentos del pago de peajes de estar dentro del sistema eléctrico

aislarlas dejarlas fuera como que es un elemento adicional pero eso no es el futuro de nuestra sociedad y ya lo dicen ellos los legisladores murcianos que hay que derogar el real decreto de autoconsumo y eliminar el denominado impuesto al sol incluir el autoconsumo compartido permitir el balance neto diferido recuperar lo que se vierte en un plazo máximo de doce meses en las facturas simplificar trámites administrativos y establecerse seguridad jurídica es decir como están haciendo ahora mismo todos

empresas y asociaciones que están involucradas en todo el tema del sector eléctrico nuestra regulación eléctrica

el autoconsumo y cada vez la electrificación más de nuestra sociedad va por ese camino y ahí es donde tendríamos que estar todos juntos porque si de aquí pretendemos que sea el gobierno vasco el que establezca esta ley eso es como con una tirita

tendríamos que seguir el ejemplo de murcia y colocar estas instalaciones que estarían fuera del sistema eléctrico

ese no es el proceso y por dar

y que me han formulado yo creo que es bueno

estamos llevando a toda la sociedad en su conjunto entonces está muy bien que el señor maeztu y bildu reivindiquen este nuevo modelo energético eso está muy bien

y ya se lo he dicho muchas veces usted establece una foto muy parcial nos enseña el lado positivo de su actitud que es muy buena venir aquí

estamos en que utilizamos combustibles fósiles todos los miembros de bildu incluidos todos sus coches veo muy pocos con coches eléctricos es decir no me hable de hechos los hechos es que tenemos una sociedad vasca con dos millónes de habitantes que tenemos que llevarlos a todos

todos estamos en esa línea pero seamos rigurosos y seamos serios me parece muy bien que hable del informe del eve del dos mil trece pero también sabe que hay otro informe en el dos mil quince en el que se dice retirada de la propuesta del real decreto con mayúsculas

de ese dos mil trece y que además dice algo muy sencillo yo como cliente que quiero ponerme una instalación de autoconsumo en casa

es que de la misma manera que yo pueda recibir en el caso de que necesite energía recibir de la red eléctrica energía y la pagaré y estaré

también cuando a mí me sobre energía lo que quiero es vendérsela a la red y si por utilizar la autopista eléctrica tengo que pagar un canon lo pagaré como pago por las autopistas pero

con lo que sea pero lo que quiero como sociedad para los ciudadanos vascos es que puedan también vender esta energía es que si no el futuro es que no va por ahí

de bloquear y paralizar lo que es la ponencia de energía sean también más rigurosos ponencia de energía eléctrica

en la ponencia de energía eléctrica desde octubre del dos mil quince es que tenemos un gobierno en funciones y los mayores problemas que tiene ahora la energía eléctrica es la regulación y pregúnteselo al parlamento europeo que le está sacando los colores ahora por el autoconsumo

a favor de cambiar esta ley sean sensatos y sean rigurosos hagamos

de la competencia que está hablando ahora con todo el sector para intentar sentar unas bases

unos consensos nuevos de todo lo que hay que cambiar en esa legislación cuando consigamos esas bases de esa nueva normativa

pero la regulación eléctrica es más del cincuenta por ciento de una ponencia de energía eléctrica y si no lo quieren reconocer

es la realidad y se lo dicen los legisladores murcianos que han tenido que para sus instalaciones de autoconsumo decir que están fuera

eso yo no quiero para los ciudadanos vascos lo que quiero

y no me pasa nada porque tenga que pagar por recibir o por dar energía y por utilizar esos canales eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

brevemente en relación al debate que se nos plantea hoy en la transaccional firmada por eh bildu y el grupo socialista

se inste al gobierno vasco a dar cumplimiento íntegro de las propuestas no de ley doscientos barra dos mil trece y novecientos barra dos mil quince relativas al autoconsumo eléctrico con balance neto

la legislatura nosotros ya nos posicionamos en relación a este debate votamos a favor de la primera iniciativa referida al año dos mil trece y en relación a la segunda

ocho meses nos abstuvimos entendemos además que esta segunda

todavía digamos que no ha sido cumplida por parte del gobierno en aquella transaccional se le pedía al gobierno la presentación de un informe

en euskadi las posibilidades de poder desarrollar dentro de nuestro ámbito competencial un marco normativo propio para favorecer la implantación del autoconsumo con balance neto y la producción eléctrica distribuida además se planteaban otras series de peticiones y otra serie de reivindicaciones que todavía no han sido

pensamos que lo más razonable es esperar a que el gobierno responda y entregue también ese informe que este parlamento exigió a través de esa

instar al gobierno poner en marcha los trámites necesarios para ir desarrollando una ley que regule el autoconsumo con balance neto

con la finalidad de favorecer el mismo y evitar costes adicionales de acceso

en varias ocasiones que estamos en contra del real decreto novecientos barra dos mil quince del gobierno de españa que estamos a favor del autoconsumo con balance neto y que estamos en contra

imposibles entendemos que esto es competencia del gobierno de españa y por lo tanto aunque podamos compartir

argumentos que nos plantean los grupos proponentes finalmente nos abstendremos ante esta transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna

efectivamente este es un tema muy manido

en su concepto de autoconsumo yo creo que el señor maeztu nos dice que este es un debate de energía nuevo debate de energía

nunca no está sobre la mesa su modelo por lo tanto no estamos debatiendo

que hablamos de energía y principalmente las iniciativas que usted trae aquí es para decir no a lo que se hace no le he visto

ninguna iniciativa en positivo la moción que presenta el señor maeztu pues insta al gobierno vasco a cumplir una iniciativa aprobada en esta cámara hace tres años

en fin ahora seguimos en las mismas en contra del decreto que ya está

no recuerdo la fecha se nos convocó a un foro de energía de autoconsumo por las empresas

y lo que allí se concluyó es que el decreto no satisface

que tardó mucho en llegarse a un texto era imposible llegar a un acuerdo entre los distintos agentes porque es verdad que los

muy contrapuestos y se llegó a un decreto que no es el mejor claro que no también compartimos eso que hay que ir modificándolo efectivamente

hay más consenso para hacer un decreto mucho más positivo para el sector que lo que había hace año y medio o dos años

algunos pues tienen mucho que decir

a un mejor decreto verdad aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad por lo tanto que se va a modificar ese decreto pues sí sin ninguna duda

pero de ahí a todo lo que se está poniendo encima de la mesa me parece bastante demagogia por su parte

hay diferentes esquemas de balance neto usted sabe que dinamarca que fue uno de los países que primero se inició

en el dos mil uno tardó diez años en regular el autoconsumo doméstico diez años no me imagino yo a usted aguantando diez años a un gobierno que no llegue a regular serían miles de iniciativas

y a los dos años modificó la normativa porque

millónarias anuales para mantener el sistema de red alrededor de trescientos millónes de euros anuales por lo tanto y ahora

mire yo creo que la experiencia de dinamarca es una experiencia que nos debe de servir y que demuestra que la regulación del autoconsumo por balance neto

pero siempre que se cuide la recaudación fiscal del sistema y no suponga una

tenemos que mantener el sistema si quiere usted estar enganchado a la red y ese sistema tiene un coste y ese coste lo tenemos que abonar entre todos

y el consumidor normal por lo tanto señor

pero yo creo que usted hace bastante demagogia con este tema sabe cómo se está modificando también en italia también en alemania y yo creo que

usted hace referencia a lo que el gobierno vasco no ha hecho no ha hecho muchas cosas efectivamente porque ha sido un gobierno plano

en contra usted no ha propuesto iniciativas en positivo

de eficiencia energética porque la mejor

y ahí ha respondido a iniciativas que hemos presentado los demás investigar

generar sistemas para guardar energía renovable para baterías etcétera creo que hay un campo importante de trabajo en ese sentido pero el gobierno vasco está respondiendo a todo lo que ha sido la legislatura

y sí creo que es un buen colofón esta iniciativa este debate para ver cuál ha sido

señor carro por un lado se lo han recordado

para reflexionar sobre el modelo energético sobre el modelo de energía

por cierto propuesta por euskal herria bildu sí que hemos hecho algunas propuestas también en positivo nuestro debate era nuestra intención era

que no existía sobre el modelo energético y poder hacer unas conclusiones pero esa ponencia a día de hoy no ha concluido entre otras cosas porque el presidente de esa ponencia hace tiempo que no la convoca parece ser no tenía mucha intención de que hubiera unas conclusiones sobre esa ponencia porque se han escuchado cosas muy significativas en la misma sobre todo sobre la necesidad ya imperiosa de hacer una transición de las energías fósiles a las energías renovables

esas conclusiones en este pleno estamos en una legislatura donde el gobierno vasco decidió renovar la estrategia energética

político ya no hablamos de un debate social sobre un tema que es fundamental para cualquier sociedad como es la energía y en este caso la energía eléctrica

ha decidido renovar revisar la estrategia energética va a pasar la legislatura y ha decidido no traerla a esta cámara

para ver estos dos temas para ver cuál ha sido la postura de su partido en este tema no debate

y se toman con empresas y no se sacan al debate político ni al debate social

de la energía en este país y todos no estamos de acuerdo con que es necesario una transición no me diga eso porque este gobierno no está

ni mucho menos seguimos apostando por un modelo de combustibles fósiles y ustedes el gobierno vasco sigue apostando por ese modelo

que esta legislatura se ha gastado el gobierno vasco en comprar acciones

gas combustible fósil el gas es muchísimo más

en esta legislatura solo la compra de acciones en un momento determinado y por una empresa concreta de gas no le voy a hablar ya de lo que nos estamos gastando en los permisos de fracking o de

otras formas de extraer gas convencional por lo tanto no me diga que ustedes están de acuerdo en una transición energética porque el dinero público y las políticas públicas no van hacía una transacción energética desde luego que necesitamos

claro que sí para hacer esa transición no podemos pasar hoy de depender de los combustibles fósiles a mañana a un modelo energético cien por ciento renovable pero podemos hacer como suecia que ha traído usted el ejemplo a colación

modelo cien por ciento renovable lo ha hecho suecia y ha decidido qué quiere decir que a partir de ahora todo el dinero público y todas las políticas públicas van a estar dirigidas

a las energías renovables y no como ustedes al gas

porque el partido nacionalista vasco en su día apostó por tener cinco ciclos combinados en la comunidad autónoma vasca que hoy en día están funcionando al quince por ciento de su capacidad pero hay que alimentarlas porque es un negocio y hay que tenerlo vivo decir ahora

de ciclos combinados de gas sería un error y sería reconocer que se equivocaron y no lo pueden hacer ustedes por último decirle que es muy duro escuchar aquí

que no se nos pida al gobierno vasco que no se le pida al gobierno vasco que legisle en aquello que no es de su competencia

porque según el estado español no es competencia de esta comunidad autónoma hacer becas de nuestro sistema educativo no es competencia de la comunidad autónoma vasca hacer ope

ley de víctimas de violencia policial que es la última amenaza del estado español de recurrir si sale aquí una ley de víctimas de violencia policial

el estado español habrá que empezar a pensar que tenemos que hacer leyes

no solo a la recentralización del estado español sino a los recortes y a la miseria que quiere proponer para este pueblo

de dotarnos de mecanismos y hacerle frente al estado español a sus recursos por lo tanto no nos diga que no
le pidamos que legislen claro que le vamos a pedir esta legislatura amaitzen joan y la siguiente legislatura si toca también que hay que legislar

a lo que nos viene desde el estado español eskerrik asko maeztu jauna sozialistak rojo andrea zurea da hitza

sí gracias presidenta mire señor carro es que lo suyo no deja de sorprendernos

sobre el autoconsumo lo que defendemos unos y defendemos otros pero yo le he preguntado o le he querido interpelar a ver si usted me podía contestar algo de todo lo que no cumplen y le voy a comprar la mayor usted dice que no quieren legislar porque es un tema competencial no estoy de acuerdo pero

aprobó y que incluso propone como propuesta hablaba de realizar ese informe que no han hecho y dice claramente nuestro ámbito competencial

y hablaba de incentivar el trabajo de la ponencia tres cosas que puede hacer este país y esta cámara nada

le reconoceré que me parece mucho más coherente que hoy voten en contra que lo que llevan haciendo a lo largo de toda la legislatura que es votar que sí para quedar bien frente a no sé quién ustedes quieren quedar bien para luego no cumplir nada el tema competencial para ustedes es una excusa cuando les conviene

son capaces de buscar la herramienta dentro de nuestras competencias para acabar llevando a cabo herramientas

y le diré el fracking esa ley a la que ustedes no se opusieron a través del voto otra cosa es lo que luego hacen en despachos y que por ejemplo a través de la competencia del agua y del medio ambiente fuimos capaces de buscar la solución para no hacer una prohibición genérica

también era competencia del gobierno de españa y ustedes al parecer si me quedo con el voto que ustedes dieron entendieron que dentro de nuestras competencias podemos buscar la herramienta para llevar algo a cabo

quieren pasar en los debates con grandes titulares pero que si uno rasca no hay nada de nada

donde los diferentes grupos parlamentarios podíamos llevar cual era nuestra postura y a partir de ahí intentar

pactar una nueva política de transición energética que es lo que se demanda y lo que hace falta en euskadi teniendo en cuenta que tenemos una dependencia enérgica de un noventa y cinco por ciento y eso ustedes es lo que no hacen y usted me dice que para justificar esto del tema de la ponencia que usted preside pero bueno que la culpa es que realmente bueno que había un gobierno en funciones

pues qué bueno que en fin que la culpa una vez más es de españa esa españa en la que luego ustedes apoyan leyes como el tema de la modificación de ley de hidrocarburos cuando les conviene quiero decir

la ponencia no se reúne desde el veintidós de diciembre de dos mil quince han pasado seis meses usted sabe que nos reunimos para pactar cómo podíamos llevar a cabo las comparecencias pendientes comprometiéndonos nosotros mismos

y usted creyendo perdone presidenta que somos tontos ha dejado pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y ni siquiera nos han convocado para decirnos

el pnv no quería que hubiera dictamen de ningún tipo porque sabía que probablemente los acuerdos políticos en esta cámara le llevarían a tragar con un dictamen que no creen porque lo que no quieren es que nada cambie porque ustedes hacen aquí cosas para llevar a madrid y hacer las contrarias

va a determinar la política económica del país y ustedes lo saben y están todo el día hablando del tema de las energías renovables pero a la hora de la verdad cero

empresas tiene de desarrollo de energías renovables que exportamos y exportamos pero que somos incapaces de poner esa energía renovable

y el tema competencial es una excusa más y un gobierno responsable tiene que ir por delante de la política no por detrás de las demandas ciudadanas y usted hablaba de sociedades avanzadas esas sociedades que cuando les conviene comparan euskadi con suecia con finlandia

y el problema es que la energía hay que darle una solución

porque la dependencia energética lejos de ir a menos podrá ir a más porque los informes dicen

no hace más que aumentar y este gobierno ha pasado cuatro años sin hacer nada eso sí

porque desde luego ni renovables ni no renovables ni nada ustedes no han hecho nada

que no nos dábamos cuenta y esto también es autogobierno ese autogobierno que tanto les gusta hablar pónganse a trabajar y digan qué quieren hacer y ahora sí que me gustaría termino presidenta en este último turno

el informe la ponencia el ente vasco de la energía por qué hay cero en la gestión del pnv

les agradezco la gran efusión y la cantidad de sus preguntas

agradezco al señor maeztu la capacidad del pnv

influir en el gobierno de españa con seis congresistas de trescientos cincuenta que tenemos ahora pues bueno es una gran labor

de tener tanta influencia luego me hablan los dos de la ponencia de energía y entonces esto iría para los dos de energía eléctrica y la pregunta les devuelvo a ustedes esta pregunta

que en la ponencia de energía eléctrica es importante la regulación la normativa eléctrica más cuando estamos viendo todos los problemas de las renovables yo creo que un ciudadano normal sabe que sí y si un gobierno está en funciones desde octubre del dos mil quince

es al grupo nacionalista vasco que puede tener cinco o seis congresistas de trescientos cincuenta hacerle responsable de que no haya gobierno en españa de que no tengamos una normativa eléctrica para que

a que nos explique cómo es esa regulación normativa yo creo que el sentido común

es muy difícil de interpretar en algunos casos me habla del modelo de combustibles

hable también de que es necesaria esa transición pero es que

para establecer un trayecto necesitamos un noventa por ciento de energía de combustibles fósiles y un diez por ciento que podremos utilizar de energías limpias pero esa es la realidad

y lo tiene usted en sus ejemplos cada vez que nos quiere hacer aquí alguna pantomima o cualquier otra historia es decir al final es su resultado cincuenta y cuatro kilómetros conduciendo un autobús o un coche con combustibles fósiles

y gracias a dios que tenemos gas y gracias a dios que conseguimos hacer

lo que es la prospección ahí en el gaviota y ahora tenemos un gran reservorio para poder meter ahí gas porque nuestras principales ciudades se están alimentando de gas natural luego es una maravilla y gracias a dios que en los años ochenta el partido nacionalista vasco

estamos hablando del gas natural ya hablaremos de fracking hoy como podemos hablar de todo yo no tengo problemas para hablar de todo pero bueno pongan otra iniciativa

me habla de competencias si yo lo que le hablo es que sean rigurosos el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco claro que está recurriendo

y claro que estamos ahí beligerantes y seguiremos estando lo que no les digo es que sean rigurosos

de la regulación del sector eléctrico hablarme y decirme que es que murcia lo están haciendo cuando lo que han hecho ha sido en su ley de renovables hacer una excepción para poder sacar

y así las puedo dejar fuera no no pongamos tiritas cuando estamos haciendo una operación a corazón abierto que es todo el tema de la regulación eléctrica no pongan tiritas

que estamos ante una operación a corazón abierto de todo el tema de la regulación eléctrica

les queda muy bien ustedes han hecho en esta legislatura una campaña maravillosa son una gran pareja

gracias presidenta uno de los más graves problemas que tiene españa es la politización de la justicia la justicia en españa está

están politizados el consejo general del poder judicial la fiscalía el tribunal supremo y el tribunal constitucional es urgente por lo tanto despolitizarla descolonizarla y profesionalizarla es decir obligar a los principales partidos políticos a sacar sus manos de los órganos judiciales

la justicia en españa que es lo que han venido haciendo durante las últimas décadas el partido nacionalista vasco ha participado del reparto de la justicia y por lo tanto

y que el partido socialista obrero español es urgente llevar acabo esa reforma como otras muchas las principales instituciones del estado están tomadas por los partidos políticos tras un proceso de privatización

que ha terminado provocando que la democracia en españa sea de baja calidad están tomados por los partidos políticos el consejo general del poder judicial el tribunal supremo

y el tribunal constitucional pero también los órganos reguladores el banco de españa la comisión nacional del mercado de valores el consejo de seguridad nuclear

o las radios y televisiones públicas esta politización de todo esta pretensión de los partidos políticos de controlarlo todo para defender desde dentro de esas instituciones sus propios intereses partidarios

funcionen mal de hecho el concepto de regeneración democrática se basa precisamente en despolitizar todas esas instituciones y hacer que las instituciones en españa funcionen como es debido como funcionan en otros países de nuestro entorno donde las cosas funcionan mejor

hay un mejor bienestar y hay desde luego mucha menos corrupción política

en euskadi dado que este estado de cosas nos afecta también a los ciudadanos vascos y por eso tiene sentido también la presentación de aquella interpelación moción en el pleno del parlamento vasco hace falta voluntad política para reformar y regenerar todas esas instituciones y llevar a cabo las reformas que españa necesita recientemente leía en un medio de comunicación que los jueces cifran

más medios si hay algo claro de lo que necesita la justicia en españa es que se necesita más medios y se necesita más independencia

una mejor justicia y más igualitaria para todos los ciudadanos españoles son decenas y decenas de casos de corrupción que afectan a la práctica totalidad de los partidos políticos upyd se ha mantenido a salvo de ese todo

cero imputados y cero corruptos diez en transparencia compromiso diáfano contra la corrupción política y múltiples iniciativas para luchar

las corruptelas la mala gestión y la corrupción política incluidas actuaciones ante la justicia cuando no nos ha quedado otro remedio ahí está el caso bankia las preferentes las tarjetas black rato y otras muchas iniciativas judiciales que pretendían hacer justicia cuando el camino de los parlamentos se nos cerraba o cuando el resto de partidos políticos

y de determinadas reformas upyd se negó a formar parte de los consejos de administración de las cajas de ahorros y se negó a estar en los consejos de administración

nos negamos también a participar de la tarta de la justicia hemos venido defendiendo múltiples iniciativas para profesionalizar la justicia suprimir los aforamientos despolitizar las principales instituciones del estado y en general perfeccionar y regenerar

con hechos no con palabras o con simple cosmética sino con actuaciones relevantes en las diferentes instituciones y como decía antes también con

u otras semejantes u otras que tenían que ver con todo lo que estoy diciendo el resto de partidos políticos han votado reiteradamente en contra aunque eso sí después en algún caso algunos de ellos proponían reformas semejantes

reformas semejantes en sus programas políticos que posteriormente otra vez dejaban a un lado en lugar de tratar de defender esas reformas en los parlamentos

observamos o atendemos a lo que es el consejo general del poder judicial ciertamente

como en su funcionamiento y es que no hay que olvidar que es un órgano con mucho poder e influencia y con funciones relevantes informe de leyes en cuestiones de política judicial

y de los magistrados del tribunal constitucional régimen disciplinario e inspección y por encima de todo el control de los ascensos en la carrera judicial a determinados puestos es decir decide quién sube y quién no la politización de una institución con tanto poder ha significado

lo que es profundamente antidemocrático y muy negativo para la sociedad en su conjunto esta politización ha provocado un deterioro muy grave del sistema judicial

una fundación internacional sin ánimo de lucro situaba recientemente a españa en el puesto sesenta de ciento treinta y tres en cuanto a independencia judicial por detrás de países como namibia bostwana malaui

sino que hay diferentes estudios que así lo vienen a reiterar permanentemente por lo tanto hay que despolitizar hay que descolonizar la justicia

el consejo general del poder judicial y el tribunal supremo y el tribunal constitucional hay que despolitizar el ministerio fiscal eliminando su dependencia jerárquica del gobierno un ejemplo práctico de absoluta parcialidad y vergonzosa politización del ministerio fiscal tendríamos

en modo abogado defensor es importante remarcar que hay un órgano como es el tribunal constitucional que aunque técnicamente no forma parte del sistema judicial

también funciona con un sistema de cuotas partidistas que lo mantiene radicalmente politizado por lo tanto también habría que despolitizar el tribunal constitucional

para eliminar la limitación de tiempo de la instrucción ahora investigación penal son muchas cosas que hay que hacer para que la justicia funcione mejor en españa

los aforamientos algo en relación a esto aprobamos hace pocas semanas en este mismo parlamento y hay que tipificar penalmente la malversación de caudales públicos y la financiación ilegal de partido políticos para combatir mejor y más eficazmente la corrupción

con todas estas reformas tendríamos una justicia más ágil más justa y más igual para todos es lo que pretendemos cuando presentamos

esta moción ciertamente en los últimos tiempos hay cada vez más partidos políticos que claman en contra de la politización de la justicia en españa e incluyen en sus programas políticos determinadas reformas para garantizar la independencia

nos parece bien que se plantee pero nos parecerá mejor cuando sean hechos concretos y sea una realidad palpable y que estas medidas sean

realidad aprobada en este parlamento o en el congreso de los diputados de momento hemos alcanzado al menos un acuerdo mayoritario con la práctica totalidad de los grupos de esta cámara y así hemos firmado una transaccional

no sabemos efectivamente si servirá para algo no sabemos si esto servirá para dar un empujón a que estos partidos políticos con representación en el congreso planteen

allí donde principalmente deben defenderse por nuestra parte hemos hecho todo lo posible aunque es cierto que estos partidos políticos han participado en el reparto de la justicia considerábamos importante que una transaccional de este tipo pudiera ser aprobada parlamento ya digo para empujar en esa dirección para ir dando pasos hacía la despolitización de la justicia y así hemos firmado una transaccional que dice lo siguiente el parlamento vasco insta a las cortes generales

a impulsar y abordar con el mayor consenso posible y con la participación y diálogo de todos los implicados todas las reformas legales que sean necesarias

constitucionales para garantizar la independencia de la justicia y que esta esté al servicio de la ciudadanía gracias a

firmantes por plasmar en este texto algo que nosotros llevamos años reivindicando ojala pueda ser una realidad más pronto que tarde

órganos que a su juicio están politizados señor maneiro pero sobre todo su moción

y por ello es a la justicia lo que este grupo se va a referir

a distintos extremos habló usted aunque hoy no lo ha dicho aquí pero sí en la interpelación del ratio de jueces por habitantes en españa

y está dentro de la media de países de nuestro entorno es más estamos por encima de países con gran tradición jurídica como italia cuyo ratio es once o de francia que es diez y en el mismo índice que suecia doce y próximos

además esta similitud en la ratio de los jueces es coherente con el hecho de que según el último informe anual sobre indicadores de los sistemas judiciales europeos elaborado por la comisión europea españa está por debajo de la media de los países de la unión en el tiempo necesario para obtener la satisfacción judicial de un derecho de

usted también que los partidos políticos plantean cuestiones en sus programas pero que luego yo también lo he dicho aquí luego no se ve en hechos ni se hace nada por la modernización de la justicia y por la dotación de medios pues bien tengo que decirle señor maneiro que en la legislatura anterior no esta tan corta

el partido popular hay datos que dejan fuera de toda duda que la justicia ha sido una prioridad para el gobierno se modernizó la justicia a través de las nuevas tecnologías plasmándose ello en la nueva ley de enjuiciamiento civil y la de enjuiciamiento criminal y destinando medios materiales para ello por ejemplo en este año dos mil dieciséis concretamente sesenta y ocho millónes de euros

de la capacidad de modificar el reparto provincial de asuntos derivando asuntos de unos juzgados a otros y ganar de esta forma en agilidad se ha incrementado notablemente la plantilla aumentando la dotación de jueces y fiscales y también para ponerle cifras el presupuesto del ministerio de justicia en este año ha crecido un siete coma veinticuatro por ciento es decir más de cien millónes de euros también dijo y lo ha repetido hoy aquí

como en todo nuestro sistema es seguro que es mejorable y luego me referiré a ello también

que estamos ante una democracia de baja calidad y

de la justicia ello implica que hay jueces que están sometidos a presiones políticas

a esas presiones políticas cuando dictan sus sentencias y habló también de la falta de independencia judicial y esas afirmaciones son graves señor maneiro

esta cuestión porque ha sido plantada muchas veces en el congreso de los diputados

si a su juicio existen jueces que no son independientes si hay casos en los que se conoce la falta de independencia de esos jueces es decir

para dictar una determinada resolución eso hay que denunciarlo porque eso es un delito reconocido en el código penal y le decía antes y se lo reitero claro que es seguro

seguro pero también es cierto que se lleva trabajando décadas para conseguir una justicia profesional independiente una justicia independiente que consiste en garantizar el derecho reconocido en el artículo veinticuatro punto dos de la constitución ese derecho a un juez predeterminado por la ley

ciento diecisiete de la carta magna tenemos un sistema de oposiciones muy exigente y objetivo una carrera profesional se dota al poder judicial de medios materiales y humanos que contribuyen a garantizar su independencia se ha reforzado en esa última legislatura también el marco normativo para asegurar esa independencia en decisiones de mayor o menor calado pero siempre destinadas a ello y les voy a

una de ellas que ha sido la modificación del sistema de responsabilidad de los jueces que han pasado a tener la misma responsabilidad que el resto de los funcionarios es decir que han tenido han dejado de que la responsabilidad recaiga directamente sobre su patrimonio con el fin de asegurar aún más su independencia y es que la justicia

los profesionales como abogados procuradores graduados sociales

responsables de la dotación de medios humanos y materiales bien pues en españa todos estos actores que componen la justicia

mucho en las últimas décadas para hacerla independiente profesional y de calidad cosa diferente es verdad

y para evitar esa percepción se necesitan datos e información se tiene que seguir trabajando y en eso estoy con usted en la transparencia también en este sector

en un elemento que empieza a tener relevancia también en otros países como es la justicia abierta conseguiremos acercar la justicia a los ciudadanos hacerla más comprensible y accesible e implantar las nuevas tecnologías como le decía antes que permitan esa accesibilidad y esa prestación de cuentas a la sociedad con el compromiso de todos los que forman parte del ámbito de la justicia usted hablaba de la politización del sistema judicial del poder judicial ponía como ejemplo el consejo general del poder judicial

debo decirle que hay que distinguir entre el poder judicial y el consejo general del poder judicial porque el poder judicial lo conforman

aparecen definidos en el artículo ciento diecisiete de la constitución y sin embargo el consejo general del poder judicial no tiene labores jurisdiccionales sus funciones están reguladas en el artículo

se encarga como bien ha dicho del gobierno administrativo y político de la institución judicial y tiene asignado funciones en materias de nombramiento ascenso inspección y régimen disciplinario pero creemos que es un error mezclar el modo de elección

poder judicial con la pureza de las resoluciones que dictan jueces y magistrados y nos vamos a referir al modo de elección de los miembros del consejo general del poder judicial que es verdad ha sido de las instituciones más reformadas desde la constitución del setenta y ocho y parece que su elección por el parlamento le quita legitimidad la elección de otras personas por parte de un parlamento le quita legitimidad nosotros creemos que no independientemente de que se pueda estudiar esa

de entrada que sean elegidos por el parlamento que es la máxima expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo español no le quita legitimidad un mayor grado de legitimidad pero como le decía eso no quita para que entre todas las fuerzas democráticas y por consenso se decida mejorar el sistema y se busquen de nuevas fórmulas que den una mayor pluralidad y una mayor eficacia en el funcionamiento tanto del consejo general del poder judicial como del resto

el partido popular llevaba en su programa promover un acuerdo con las fuerzas políticas y con todos los que se quisieran sumar a él

y reforzase su labor como órgano de gobierno de los jueces nosotros presentamos aquí una enmienda

al gobierno de españa a impulsar y a llevar al parlamento una estrategia nacional de justicia

del poder judicial del ministerio fiscal de los operadores jurídicos es decir profesionales órganos colaboradores y órganos administrativos que prestan servicio

así como de las distintas fuerzas políticas que representan a los ciudadanos que dicha mesa analizase el cumplimiento de la mencionada estrategia y realizara recomendaciones oportunas para el desarrollo de la misma esta enmienda que yo presentaba hoy aquí

electoral programa que no solamente fue refrendado mayoritariamente el veinte de diciembre sino que todavía ha sido más refrendado ahora el veintiséis de junio es necesario un gran acuerdo un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas porque asuntos de calado como este se tienen que hacer por consenso pero no solo de las fuerzas políticas también de las administraciones implicadas y de los profesionales de la justicia y como le decía de todos los operadores jurídicos

la justicia española por eso nosotros hemos firmado esa enmienda transaccional porque es verdad que hay ámbito de mejora y es verdad que en un asunto como este que debe de ser
un acuerdo de estado lo suyo es ir todos juntos de la mano y por consenso nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

gracias presidenta buenos días señorías buenos días lehendakari bien hoy último día de pleno ordinario de esta

este parlamento vuelve a debatir una moción consecuencia de interpelación del portavoz de upyd por la que se solicita

que garanticen la despolitización de la justicia como ustedes ya saben a nosotros el grupo parlamentario socialista siempre nos han interesado mucho todas esas

en este parlamento durante esta legislatura lo han sido a instancias precisamente de nuestro grupo sobre todo

se dirigen a un objetivo claro que es el de señalar a la justicia como un servicio público esencial como un servicio público a la orden de la ciudadanía y esto no es por casualidad

nosotros tenemos un compromiso interiorizado y firme que tiene mucho que ver

garantía de la defensa de los derechos y las libertades de las personas

interpelación de la que deviene esta moción hablaba que la despolitización de la justicia en españa se arreglaría con cinco o seis medidas y entonces

yo le agradezco muchísimo el tono de su intervención de hoy porque ha sido un tono conciliador y amable porque en este tipo de cuestiones ha habido a veces que el debate ha sido más bronco pero el planteamiento que ha hecho usted con esta moción me lleva a afirmar que como sospechaba usted ha traído aquí este asunto no para hablar de la despolitización

independiente sino para intentar repartir un poquito de estopa

y hacer lo de siempre es decir alzarse usted como el único defensor el único adalid del mundo mundial

y unir corrupción y justicia es un poco

no tengo muchas ganas de bailarle el agua y no le voy a dar palmas al pregonero pero he de decir que hay muchas veces que usted tiene una capacidad

chiste si me permite presidenta de hacer amigos en diez minutos cada huevo y destrozar el valor del acuerdo en dos

a pesar de que hay un acuerdo en fin dispara a todo lo que se mueve y eso aunque hoy repito el tema ha sido muchísimo menos bronco al final siempre usted deja caer que ustedes

fin pero me entiende usted perfectamente lo que le quiero decir en cualquier caso los socialistas

y que propondremos en la próxima legislatura para modificar sustancialmente esa justicia de la que le hablaba al principio esa justicia al servicio de las personas

en los últimos tiempos especialmente como decía usted algunos órganos constitucionales y organismos reguladores también cuya independencia e imparcialidad está siendo cuestionada y por eso lo que toca es hacer reformas y toca modificar el procedimiento de su designación parlamentaria fundamentalmente y hacerlo mediante convocatoria pública

fundamentalmente profesional con publicidad de los informes de evaluación con sesiones de audiencia etcétera y no solo deberá ser esto de aplicación para el tribunal constitucional para el consejo general del poder judicial y para la fiscalía como decía usted también corresponderá efectivamente al tribunal de cuentas a la defensoría del pueblo a la comisión nacional del mercado de valores a la comisión nacional de mercados y competencia a la autoridad de responsabilidad fiscal

de la junta electoral central al consejo estatal de medios audiovisuales por ejemplo y también toca reformar efectivamente la ley orgánica del poder judicial para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del propio poder judicial corregir las disfunciones del consejo general

sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes composición colegialidad y pluralidad y dicho todo esto que yo creo que sí son medidas no cinco o seis igual más de las que se hablaban entonces vuelvo a donde empecé y que además creo que es lo más importante

los socialistas queremos una justicia que garantice nuestros derechos y el ejercicio de nuestras que proteja nuestros derechos los derechos y eso no es otra cosa que un servicio público que se constituye

nos interesa sobre todo la justicia señor maneiro de todos los días

la que resuelve las demandas de la gente la que satisface sobre todo el ejercicio de nuestras acciones

esa justicia que se basa en la igualdad de oportunidades y en la prevención de la conflictividad social queremos una justicia que garantice la tutela judicial

ante los daños que podamos sufrir los y las ciudadanas una justicia que garantice realmente el recurso justicia gratuita que es el único horizonte de protección de las personas más vulnerables y ello solamente se puede hacer aumentando los recursos presupuestarios para garantizar esa tutela judicial efectiva de la que tanto hablamos

un país no es verdaderamente decente y toca cometer cambios de calado que mejoren el derecho a la justicia gratuita tanto para los demandantes como para los profesionales

y lograr definitivamente una dignificación retributiva del turno de oficio y digo retributiva porque el turno de oficio ha sido digno de siempre y lo digo con conocimiento de causa una justicia

los litigios y las controversias ofreciendo seguridad jurídica queremos una justicia accesible

de manera justa y en un tiempo razonable que provea

y un servicio eficaces y eficientes con medios personales y materiales suficientes y con plena incorporación de las nuevas tecnologías toca también reorganizar la planta judicial de forma racional para que el nuevo mapa judicial a las nuevas realidades sociales y territoriales preservando siempre la justicia de proximidad y toca también seguir defendiendo el registro civil como un servicio público y gratuito que mira hay que ver qué empecinamiento con él con el registro civil en fin seguiremos haciéndolo

esto es lo que hay que hacer para que la justicia sea de verdad justa lo que hay que hacer es darle a la ciudadanía lo que se merece y lo que se merece es un servicio público a su orden y yo

esta enmienda transaccional pero las principales razones son estas la de justicia al servicio de la ciudadanía

hemen argi eta garbi aurreko interbentzioetan geratu dela decía que escuché con interés la interpelación del señor maneiro estoy de acuerdo que no es una tacha de origen solamente la que existe es decir cómo se eligen los que van a conformar distintos órganos del poder judicial es decir

que te tienes que preocupar más por si en esa especie de sorteo te van a tocar una mayoría de

las posiciones más que las razones o los argumentos jurídicos que puedas incorporar decía el señor maneiro y yo ya he repetido están tomados por los partidos políticos estoy de acuerdo incapacidad para

correcto los partidos lo contaminan todo estoy de acuerdo esta politización ha provocado un deterioro muy grave del sistema judicial bien además introducía el dato este interesante de que la justicia española se encuentra por detrás de países como namibia o botsuana

han terminado provocando que la democracia en españa sea de baja calidad correcto pero yo iría un poco más allá iría un poco más allá

al poner esos puestos en los órganos de decisión de los tribunales o en sus órganos de control no creo que se está buscando impartir justicia sino que se está

en decisiones de justicia pero altamente

o mediar en definitiva en política y es algo que en este pueblo hemos conocido de manera intensa y de manera profunda es algo sobre lo que este parlamento también ha discutido sobre lo que hemos debatido y no voy a traer otra vez ese catálogo de agravios o de agresiones de la justicia española a a derechos civiles básicos que han sido en los últimos años vulnerados y sobre los cuales como digo hemos debatido y sobre los cuales también hemos adoptado resoluciones pero decía que coincidía en el análisis porque no parece lógico

para un servicio que se denomina o que se llama o que se intitula independiente imparcial o neutral lo que yo no sé

explicaciones el señor maneiro ve que con los compañeros de viaje que se ha

nos trae hay posibilidad real de esas reformas que él plantea usted cree que lo harán

sin mera cosmética nos ha dicho en el primer turno está satisfecho porque a mí no me satisface yo creo que la posición que ustedes hoy nos traen no llevará a nada no va a tener ningún tipo de objetivo y

los cofirmantes no tienen tampoco el objetivo que usted presentaba esan behar nuen baita ere sorpresa handiz

ahora señor maneiro preocupado sí pero tampoco hasta los extremos que usted en su habitual tremendismo mencionaba decía que es uno de los problemas más graves de españa

y en su interpelación sobre este tema llegó a autocalificarla como una de las interpelaciones más importantes que se habían realizado en las últimas semanas en este parlamento

en esta que usted mismo califica como una de las más importantes presente su primera y única iniciativa parlamentaria justo finalizando la presente legislatura cada uno sabe cuál es la motivación real de sus iniciativas horrekin batera esan beharra daukagu baita ere

que instaba a las cortes generales y al gobierno de españa a impulsar un profundo debate y a la búsqueda de los consensos más amplios

sobre las medidas a adoptar para garantizar la independencia de la justicia y también tiene cabida la enmienda finalmente transada con el proponente el grupo socialista y el grupo popular como le decía el consejero señor erkoreka esto no se hace de prisa y corriendo con urgencias como planteaba en su

entre los principales grupos parlamentarios fíjese si es compleja la cuestión que hasta su exlíder en el congreso de los diputados la señora díez a la que se ha hecho referencia aquí que esta sí que presentó varias iniciativas en el congreso

al puro estilo maneiro la misma varias veces sobre únicamente sobre la modificación del sistema de elección

relativa a la despolitización del tribunal constitucional por ejemplo que también usted menciona tanto ella como usted aquí confunden como le han dicho

con el tribunal constitucional órgano que no forma parte stricto sensu

así se lo explicaron en el congreso todos y cada uno de los grupos políticos a la señora díez

emilio olabarría y también el señor erkoreka lo puso de relieve

nosotros tenemos claro que una cosa es la justicia la administración de justicia que es la impartida día a día

hombres y mujeres de las que no tenemos ninguna duda de su profesionalidad

lógicamente como personas tendrán su adscripción o su ideología pero en la labor

creemos que son responsables son profesionales y son

y de amparo para utilizarlos y en alguna ocasión y aquí se ha puesto de manifiesto en el debate que

el pasado año estos mecanismos de protección que no fue a raíz de críticas del partido nacionalista vasco precisamente cuando los magistrados solicitaron el amparo del consejo

y magistrados en la aplicación del día a día de la justicia si cree que no son independientes que no son imparciales y que están

y que eso les condiciona en la aplicación de la ley podíamos hablar también de las asociaciones profesionales también las asociaciones profesionales queramos o no tienen su adscripción ideológica

para que en la profesionalidad se rijan por la aplicación del principio legal

que es el órgano político de gobierno del poder judicial que es un órgano que no ejerce funciones jurisdiccionales esas funciones la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado

y donde nos plantea a usted son los mecanismos de elección y lógicamente aquí hay distintas opiniones distintas opciones y todas ellas

de tres quintos pero que no se base solo en mayorías sino que se base en consensos

todo lo contrario por tanto conceptos distintos independencia al poder judicial de la administración de justicia

órgano de gobierno del poder judicial en su moción mezclaba realidades muy distintas y no todas ellas pueden tener un tratamiento homogéneo

que es un tribunal que claramente está politizado y no porque lo dijese él sino lo dicen

y además centralizado centralizado politizado y centralizado por tanto creemos que en la transaccional que hemos firmado es tan amplia que permite ser suscrita como así ha sido por distintos grupos parlamentarios incluso yo creo que hasta

la podría apoyar por otro lado del tenor literal de su moción parece que el señor erkoreka en su interpelación sobre esta materia le convenció ya que en su momento está planteada en otros términos

y ese cambio de enfoque creo que es acertado si bien y me ha sorprendido todo lo demás ha sido una reproducción casi literal de su intervención en el pleno de control del día tres de junio

por el conjunto de medidas que pensaba tomar o ayudar a tomar el gobierno vasco para despolitizar la justicia en el conjunto de españa que ha entendido que es un asunto que al menos al menos actualmente trasciende con mucho del ámbito de la comunidad autónoma vasca y en consecuencia de su gobierno y de sus competencias

porque nosotros euzko abertzaleak reivindicamos un poder judicial propio vasco

inicialmente la transferencia de todas las competencias en materia de justicia para euskadi no solo lo que se denomina la administración con minúsculas de la administración de justicia

seguro que aquí en euskadi como en otras materias lo vamos a gestionar mucho mejor que en el estado español no tengo ninguna duda y los ciudadanos y las ciudadanas vascas tampoco comenzaba mi intervención manifestando que compartíamos su preocupación por la politización de la justicia y voy a terminar manifestando también otra preocupación quizás mayor

creo que sabe mucho por un lado hay quienes tratan de criminalizar al adversario político judicializando actuaciones estrictamente políticas recuerdan el caso del lehendakari ibarretxe

por señalar dos de los casos más relevantes pero hay muchos más la lista es interminable por no hacerles muy largo esta exposición me ceñiré en lo de ayer

de los comedores escolares señores del pp denuncias en vía penal por actuaciones administrativas

no vale todo esto es totalmente inaceptable y por otro lado padecemos también con el estado la constante judicialización de problemas de naturaleza

el portavoz del gobierno en treinta y tantos conflictos esta legislatura conflictos ante el tribunal constitucional y ante los órganos jurisdiccionales

para ello es necesaria capacidad de diálogo y negociación política que visto lo visto parece que es algo que escasea en el panorama político español

decía la señora llanos que la justicia ha sido una prioridad para el pp

legislatura y efectivamente algunas reformas se han llevado a cabo pero queda la fundamental que es la despolitización de la justicia que por otro lado ustedes han reivindicado en el pasado y alguna de esas propuestas que hemos escuchado hoy aquí

en sus programas electorales por lo tanto esa es la verdadera reforma de la justicia que queda pendiente en españa la despolitización la descolonización

importante precisamente es esa la que ustedes no quieren llevar a cabo no es ningún invento de upyd es cierto que llevamos años planteando este

internacionales que sitúan a españa como uno de los países donde la justicia es menos independiente de los partidos políticos y antes he señalado un informe

como un asunto esencial el tema de la forma de elegir a los miembros del consejo general del poder judicial el propio señor gallardón en su momento planteó un cambio en la forma de elección de los miembros del consejo

fundamental despolitizar este órgano que está convertido a día de hoy en campo de batalla partidista y esto no es una percepción de upyd es una

para elegir cargos como presidentes de audiencias y tribunales superiores son algo conocido y comentado públicamente y el vocal que se sale de esos bloques

una opinión esto es analizar la realidad ver qué es lo que ha ocurrido en españa en los últimos tiempos

compararlo con otros países más desarrollados de nuestro entorno y a partir de ahí plantear soluciones el consejo general del poder judicial tal y como ustedes saben mejor que

por eso es tan importante que no esté en manos de los partidos políticos para que esas funciones no estén condicionadas por los intereses de los propios partidos políticos señora gallastegui yo no he tratado de repartir

realidad del país y los hechos me dan la razón por una causa

todos ustedes sin ningún tipo de excepción han terminado reconociendo que en españa la justicia no es independiente y que está politizada

por los principales partidos políticos no he repartido estopa es decir he descrito la realidad

y que han participado de esa tarta de la justicia también el partido nacionalista vasco y que ninguno de estos partidos políticos ha planteado en sede parlamentaria ninguna

que usted ha citado señora gallastegui no ha planteado en el pasado ninguna reforma para modernizar la justicia y hacerla más independiente pero vamos no he repartido

atacar al resto de partidos políticos pero evidentemente ustedes son los principales partidos políticos pp y psoe de cómo funcionan las cosas en españa para bien y para mal y en españa hay muchas cosas que funcionan muy mal por lo tanto es normal que ustedes sean los responsables de todo eso que funciona tan mal señala algunas medidas

perfectamente algunas de esas reformas que usted ha planteado señora gallastegui las hemos defendido nosotros en el pasado y siempre han votado ustedes en contra y el partido popular también al grito de demagogos y antipolíticos pero está bien que

incluso añadan otras más de su propia cosecha todo lo que sea bueno para regenerar la democracia a nosotros nos parecerá estupendamente en relación al consejo general del poder judicial ya el partido popular llevaban en su programa

del consejo general del poder judicial para que conforme a la constitución

se señaló en su programa y el partido socialista obrero español señaló también que

judicial no podía seguir negociándose entre partidos políticos y que había que despolitizar el órgano por lo tanto todos de acuerdo han planteado en los últimos tiempos algunas reformas están en sus programas electorales ahora lo que queremos es que efectivamente se apliquen del partido nacionalista vasco no conocemos ninguna medida referente a tratar de despolitizar la justicia en españa pero en todo caso si ustedes tienen

no hay ningún problema en fin todo esto es lo que yo creo que hay que

han pasado treinta años pero en fin quizás podemos otros treinta yo creo que es una reforma que hay que hacerla cuanto antes

pero en fin cuanto antes mejor y que se juzgue a determinados dirigentes políticos es algo que ponen encima de la mesa que todos los ciudadanos
debemos ser o deberíamos ser iguales ante la ley amaitzen joan maneiro jauna por eso
en determinados momentos se puede juzgar al señor ibarretxe o al señor mas

ustedes han tenido ocasión de plantear todas sus reivindicaciones y de plantar todas sus propuestas saben qué es lo más

un servidor que todos ustedes han reconocido que la justicia en españa está politizada bien por lo tanto se reconoce que algo funciona mal

para que la justicia en españa sea realmente independiente ágil e igual para todos

que ha conseguido upyd en el pleno de hoy señor lehendakari que todos los partidos políticos sin excepción hayan reconocido que la justicia en españa está politizada

siempre han dicho que no estaba politizada y que esas reformas que planteaba upyd eran
innecesarias eskerrik asko maneiro jauna y en relación al señor arzuaga decía si eskerrik asko denbora agortu zaizu

qué compañeros de viaje he elegido señor arzuaga los compañeros de viaje que hay en este parlamento no tengo otros no había otros es decir el partido popular

si creo que harán o llevarán a cabo estas reformas creo más bien que no
pero al menos se han mojado y han reconocido que la justicia en españa está politizada gracias eskerrik asko maneiro jauna

señor maneiro cómo le gusta a usted hacer además de tremendismos como se ha dicho aquí maximalismos cómo le gusta

que todos hayamos reconocido sea upyd qué hubiéramos hecho en esta legislatura sin usted señor maneiro de verdad

todos los grupos políticos claro que se puede mejorar pero no se puede hacer maximalismos

que la justicia no es independiente en españa porque es falso es que no es así

si hubiese conseguido ganar otro grupo político si realmente los jueces

pero desde luego con quienes han gobernado hasta ahora acceden a través de oposición y profesionalmente no se puede

que españa es una democracia de baja calidad sabía que iba a ser utilizada por eh bildu y de hecho ya ve

ha ponderado mucho de sus criterios porque no hay nada más que le guste a eh bildu que decir que las instituciones españolas

contaminadas y que tienen baja calidad y usted ha contribuido a ello y no es así que hay ámbito de mejora claro que sí

que es verdad que hubo un proyecto de ley para modificar el nombramiento de los miembros del consejo general del poder judicial sí lo que pasa es que como se lo he dicho en este asunto lo fundamental

lograr un consenso y claro que el partido popular podría haber

y yo creo que esa era la enmienda que nosotros llevábamos precisamente

que en esa estrategia no solamente se modifique la

que es uno de los aspectos sino que se consiga mejorar en todo para conseguir efectivamente una justicia más eficiente más ágil

está consagrado constitucionalmente pero ello no significa echar por tierra todo lo que ha habido anteriormente

ha sido nefasto ha funcionado muy mal no había independencia solo había politización la justicia estaba tomada

no es así eso es hacer maximalismos y maximalismos falsos señor maneiro falsos y decía el partido nacionalista vasco cómo no que

ustedes siempre dicen que cualquier cosa que ustedes hacen mucho mejor pero bueno

llegar las políticas activas de empleo a euskadi y vamos aquí el empleo iba

y usted hablaba de la despolitización de los órganos judiciales y de las instituciones

no es un tribunal aunque tenga el nombre pero el tribunal vasco de cuentas públicas

es un ejemplo de politización absoluta absoluta

de quien tiene que controlar las cuentas de la diputación foral de bizkaia a quien ha sido

es un ejemplo de despolitización de las instituciones ese es el concepto vasco de despolitización el vasco no el concepto nacionalista del partido nacionalista vasco de despolitización pues ya le digo como ejemplo

pero el poder judicial en euskadi ha estado durante mucho tiempo su independencia claramente coartada

muchos jueces han tenido que llevar escolta incluso quien fue profesor mío el señor lidón fue asesinado por una banda terrorista y le afectó

del poder judicial y todavía estoy esperando a que usted censure ese ataque a la independencia del poder judicial

sí gracias presidenta buenos días de nuevo señorías a ver señor maneiro

ningún problema en hacerle feliz a usted es más me encanta que todo el mundo sea feliz

considerar que todo el mundo en esta tribuna hoy ha llegado a la misma conclusión que usted

yo creo que no he utilizado en ningún momento la palabra despolitización y he estado hablando siempre de una justicia al servicio de la ciudadanía y creo que le he dicho que lo que le iba a plantear son las medidas que nosotros tenemos y que vamos a proponer en la próxima legislatura

para mejorar sustancialmente esa justicia que queremos

y no es el único una ocasión estupenda para decir exactamente cuáles son las medidas que ustedes proponen porque como le digo

no le he oído de entrada hoy decir ni una sola medida ni una sola usted ha hablado de que hay que hay que hay que y eso me da qué pensar y vuelvo a decir que si usted no ha salido aquí para dar estopa

pero lo cierto es que no ha hablado del fondo de la cuestión para nada usted se ha dedicado a decir que los órganos de gobierno y los órganos judiciales están copados por una serie de partidos es decir usted ha venido aquí a hablar de su libro

yo encantada de colaborar en su felicidad y eso es algo que no es de ahora es de siempre

y para ratificar eso ha dicho una cosa que no sé si es por la traducción o no pero es absolutamente incorrecta

una enmienda de transacción en la cual se acuerde no criticar a la justicia jamás lo que sí hemos dicho por activa y por pasiva y lo repetiremos siempre y lo vuelvo a repetir yo aquí hoy

la justicia en un estado democrático se respeta se respeta siempre y se utilizan los medios y los sistemas que haya de recurso si uno no está de acuerdo con lo que los jueces dicen hasta que llegue

la firmeza de las sentencias como usted sabe y

de conocimiento jurídico por lo tanto también me ha sorprendido digamos de manera un poco

no han hablado ustedes de la reforma constitucional estamos hablando de las reformas

y por lo tanto va de suyo que como llevamos diciendo muchísimo tiempo vamos a instar todas las reformas constitucionales que sean necesarias para adaptar nuestra norma suprema a la realidad actual de nuestro país

en su enmienda de totalidad y luego

lo que dice que quiere hacer en su enmienda de totalidad y no le he oído decir de eso nada usted se ha tirado aquí el tiempo de su intervención para

decirnos a los demás lo que no vamos a hacer

es decir defienda usted lo que tiene que defender y nosotros haremos lo que tengamos que hacer

para esas reformas constitucionales o para muchas reformas en las que va de suyo sobre todo la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía

representantes en el congreso que pueden ayudarnos muchísimo le invito a que se tomen en serio efectivamente los derechos las libertades

y nos apoyen en esa serie de medidas gracias eskerrik asko gallastegui andrea arzuaga jauna

posizio honi termino haciendo una mención

hacia las dos posiciones que hoy están encima de la mesa si se iba a decantar hacia esa solicitud de reformas legislativas que cada cual interpreta a su manera o si se iba a decantar a una solicitud de un sistema de justicia propio

de defensa de una justicia vasca no de una administración de la administración que es lo que hay hoy sino una administración de justicia vasca no lo aprovechó y yo me temía que era por tal vez la actitud que está demostrando

la nula proximidad que está mostrando hacia los registros civiles

la administración de justicia o las competencias sobre la administración de justicia

del gobierno vasco o tal vez del pnv una posición que desde mi punto de vista adolece absolutamente de cualquier tipo de ambición cierto es también que el señor zorrilla hoy ha sido más explícito lo ha reivindicado pero

ha preferido luego con su firma caer decantarse en el lado

en vez de hacer una reivindicación como era lo que yo planteaba de un sistema de justicia vasco

cercano euskaldun con jueces naturales para una ciudadanía de hoy y aquí eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak

sí eskerrik asko presidente andrea señor maneiro lo de las prisas corriendo y demás no es que lo haya dicho yo en su moción que da origen a este debate dice a impulsar de manera urgente por eso nosotros a esa manera urgente le contrarrestábamos con un profundo debate por eso de que las prisas eran malas consejeras por otro lado no me ha contestado

la de que si usted cree que los jueces y magistrados hombres y mujeres que a día de hoy

su profesionalidad y su independencia usted no se ha manifestado al respecto y por último hablaba de nuestras propuestas bueno nuestras propuestas las presentaremos como hacemos siempre donde haya que presentarlas

de control manifestó que con cinco seis siete reformas esenciales sería suficiente para su objetivo pues como le dijo el señor erkoreka preséntelas preséntelas sus propuestas a día de hoy no las ha presentado ni aquí ni en el congreso la señora díez solo ha presentado una de manera reiterada y decirle también que nuestras propuestas

ese partido al que a usted le gustaba ya no tanto le gustaba denominar viejo viejo con más de ciento veinte años

aquellos que tienen fuertes y sólidos con una amplia base social y aquellos basados en personalismos que caducan con la persona pues nosotros el pnv siempre ha trabajado y ha aportado con unos y con otros de manera responsable y legal para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas

en definitiva y en esta materia también lo seguiremos haciendo respecto a la señora llanos bueno me decía que cómo no el pnv todo se hace aquí mejor que en madrid pues bueno qué quiere que le diga yo no es una perfección subjetiva cuando

la situación económica la segunda y el fraude y la corrupción política en tercera

y cogiendo los datos del sociómetro vasco realizado en marzo del dos mil dieciséis a la pregunta sobre la satisfacción con el funcionamiento de la democracia ya que hemos dicho que la justicia es un servicio público esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático pues en euskadi se consideraba

el sesenta y dos por ciento lo consideraba muy satisfecho o bastante satisfechos

estado español que igual se hacen las cosas mejor pero la sociedad vasca no piensa así muy satisfecho o bastante satisfecho de cómo funciona la democracia y entre eso estará la justicia

que opinaba que no no es una percepción subjetiva mía ni de este partido es una opinión con datos señora llanos

ha especificado que era el actual y que como aquel está elegido por este parlamento que es el competente para ello y que como aquel cumple los requisitos legales para su nombramiento y en este caso tendrá que cumplir las normas que rigen el tribunal vasco de cuentas públicas y por tanto tendrá que abstenerse si hay algún tema que pueda afectar a la institución que anteriormente

finalmente y centrándome porque esto ha sido un matiz que ha dejado caer en lo que vamos en la justicia es gracioso que el partido popular haya introducido en esta enmienda de transacción una frase que es con la participación y el diálogo de todos los implicados el partido popular

aquí hemos tenido hemos debatido un montón de leyes que se han aprobado

de un montón de leyes que el partido popular ha tenido a los implicados

en diversos estatutos dónde están señora llanos dónde están a día de hoy han sido totalmente obviados y para terminar pues bueno

y yo creo que si usted se lee hay una ponencia

ha desarrollado una ponencia de autogobierno en la cual hay unas propuestas de los partidos

relativas a este tema tanto de eh bildu como del partido nacionalista vasco son en la misma línea desarrollar un sistema propio de administración de justicia con a mayúscula siéntanse a hablar y acordar porque hay muchas cosas sobre las que acordar besterik gabe eskerrik asko